ezer oparituko recuerdo que usted en la conferencia que hace dos días ofreció en bilbao

todo lo que tengamos que hacer lo haremos nosotros y así ha sido

de euskadi las cosas no son por casualidad son por causalidad

ha dado como fruto un modelo propio el modelo vasco de desarrollo humano sostenible que usted tantas veces defiende

claramente en esta legislatura han marcado quince objetivos que reiteradamente usted nos está marcando cuáles son los niveles de logro una estrategia un marco económico financiero definitivo planificación a medio

y en este momento lo que toca es presentar el proyecto de presupuestos nik eskertuko neuskizu gaurko honetan gure galderaren bitartez

las directrices económico presupuestarias a las que ha hecho mención señora gorospe las directrices del gobierno vasco están alineadas con el modelo de desarrollo humano sostenible y la agenda euskadi basque country

con esta orientación destaco diez líneas básicas y prioridades

es realista y responsable no afronta recorte alguno es moderadamente expansivo parte de la previsión de crecimiento del dos coma seis por ciento de la economía vasca

anticipada adelanta dos años el compromiso de alcanzar el déficit cero pone las bases para la recuperación del poder adquisitivo de los salarios públicos los gastos de personal experimentarán un incremento global del cuatro por ciento recupera los niveles de inversión pública perdidos la inversión crecerá al menos siete puntos sobre todo en educación en salud

dedica una especial atención a la educación incorpora los acuerdos alcanzados con los sindicatos y prioriza las inversiones en infraestructuras educativas apuesta por la innovación garantiza un crecimiento del cinco por ciento en la aportación pública en investigación y desarrollo garantiza el compromiso con las familias perceptoras de la renta de garantía de ingresos la cuantía

subirá tanto como los salarios públicos tanto como los salarios públicos incentiva la inversión privada realiza un mayor esfuerzo

y las transferencias incrementa la aportación a las políticas de igualdad asume los objetivos del plan operativo de la lucha contra la brecha salarial

de la inversión pública manteniendo el compromiso social y garantizando la consolidación fiscal este es el presupuesto de la inversión

las políticas sociales y el sistema vasco de bienestar eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako bigarren puntua galdera

ontziola honen etorkizunean konprometitzeko la pregunta es clara

y nos permita buscar inversores de futuro con mayor tranquilidad continuar

y garantizar la flexibilidad en la aplicación de los derechos de los trabajadores eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna casanova jauna zurea da hitza

conozco lo que ha hecho el gobierno en defensa de la naval y yo no he dicho ni en público ni en privado ni por escrito ni en esta tribuna que el gobierno no esté haciendo nada lo que creo es que a estas alturas lo que creo es que a estas alturas es más que evidente que lo que está haciendo no es suficiente

que siguiendo haciendo lo mismo vayamos a obtener un resultado distinto y tenemos el tiempo en contra

por su dimensión por el volumen de empleo que genera por el sector en el que se ubica un sector del cual es prácticamente un subsector es el único representante de construcción de grandes buques con alto componente tecnológico y alto valor añadido y por su ubicación

por décadas de desindustrialización y también de olvido y abandono por parte de las instituciones

por dimensión por sector y por ubicación una empresa extraordinaria que está en una situación extraordinaria y que requiere medidas extraordinarias y yo creo que es el momento que este gobierno mande una mensaje claro

un mensaje de compromiso también económico y de disposición a participar con dinero y con inversiones en el futuro de este astillero

de que este gobierno respalda el futuro de la naval necesitamos seguridad y sí el señor

van oord necesita seguridad y sería positivo un mensaje en ese sentido del gobierno vasco

puede entender que le va a dar seguridad un compromiso de acompañamiento por parte del gobierno vasco la plantilla también requiere de esa seguridad porque está en una situación crítica y desesperada

también requieren de esa seguridad no se excuse y aunque ahora no lo ha planteado en otros momentos así ha sido en que la normativa de la unión europea no permite realizar este tipo de inversiones

quien no quiere hacer algo busca una excusa quien quiere hace algo busca un camino

usted y su gobierno deben buscar un camino dentro de la legalidad que existe

para hacer las aportaciones económicas necesarias para mantener abierto el astillero o para acompañar a un potencial inversor que quiera comprometerse con el futuro

están viendo ustedes en estas pantallas a parte de mi imagen un reloj un reloj con una cuenta atrás y los que subimos a esta tribuna somos muy conscientes del tiempo también lo tenemos aquí delante

lo están viendo una cuenta atrás que también se ha activado en el astillero de la naval hay dinero en caja para pagar la nómina el día diez de noviembre

ha dicho que los empleos durarán lo que dure este mes este

en breves instantes y la señora presidenta me va a cortar el micrófono

está en naranja está en naranja muy oscuro casi rojo

el futuro la esperanza y la posibilidad de que la naval siga abierta eskerrik asko eskerrik asko

zatirik erosi mire recuerdo la misiva remitida por la dirección de la competencia de la comisión europea el dieciocho de septiembre del año dos mil diecisiete

del riesgo de estar incurriendo en una ayuda de estado señor casanova no pretenda engañar a nadie y menos

actuar con ayudas de tipo financiero en una situación de estas características por normativa europea además las condiciones en las que se privatiza la naval también dificultan las acciones por parte del gobierno

un informe que fundamente lo que podemos hacer y lo que no es posible y lo estamos preparando y demostraremos que esto que estamos diciendo es así mire

podríamos plantear cualquier otra cuestión la entrada en el accionariado de la futura empresa tras la salida del concurso señor casanova tras la salida del concurso reitero

tenemos que tener mucho cuidado con las acciones que llevamos a cabo para que no se consideren ayudas de estado la sola mención a esa posibilidad en el futuro por parte

el año pasado condujo a la apertura de expediente informativo en competencia europea y la solicitud de aclaraciones muy detalladas el gobierno vasco está actuando y nuestra prioridad se centra en dos cuestiones

y atraer inversores que garanticen la viabilidad futura de la naval

a partir de ahí en ese escenario contando con un proyecto viable y de carácter

sí podría analizar su participación siempre claro está de acuerdo con los inversores lo que en el pasado no ha sucedido señor casanova cuando se ha intentado siempre claro está en los términos que la legislación comunitaria que establece para estos casos y siempre claro está contando con

con los presupuestos la posibilidad del enorme fracaso político que representaría una prórroga presupuestaria sobre vuela en el ambiente

qué está dispuesto a cambiar de su rumbo de las políticas de su gobierno para sumar

cuánto está dispuesto a mover cuánto está dispuesto a ceder eskerrik asko eskerrik asko

eskerrik asko legebiltzarburu andrea martinez jauna el gobierno afronta la búsqueda de apoyos con dos premisas esta es una negociación

y estamos abiertos a la negociación y acuerdo con todas las fuerzas políticas zuzen zuzenean ezagutzen duzue eusko jaurlaritzaren proposamenaren oinarria

aurrekontuaren zehaztasunak ustedes conocen el detalle del cuadro presupuestario presentado por el propio consejero esperamos su análisis

y trasladar sus propuestas a las partidas presupuestarias concretas eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna martínez jauna zurea da hitza

lehendakari de verdad no tiene nada que ver

por ejemplo el rescate público a la naval en los presupuestos no tiene no es necesaria una partida de los presupuestos por ejemplo para adquirir los activos de un astillero en proceso de liquidación no tiene nada que ver la fiscalidad

para plantear el gasto de los presupuestos lehendakari de verdad no tiene que ver con los presupuestos las políticas de empleo las políticas de vivienda o de inclusión social

si ustedes quieren se cierran a acordar sobre la base de repartir treinta o treinta y cinco millónes

si se niegan a moverse a modificar las políticas de empleo de vivienda de inclusión social

pues entonces se están imponiendo ustedes la prórroga pero en elkarrekin podemos no tenemos ningún miedo en llegar a acuerdos con ustedes ez daukagu beldurrik

en llegar a acuerdos siempre y cuando sean positivos para la ciudadanía y para euskadi por eso mismo desde la izquierda vasca les ofrecemos un marco de negociación de los presupuestos muy similar al que se está siguiendo en madrid con el gobierno de pedro sánchez por parte de unidos podemos hau da gure eskaintza

izatea hemen parekoa lehendakari lo oímos una vez más

que no se concretan en nada nosotros no vamos a mezclar el debate presupuestario con autogobierno como hacen partido popular y bildu le ofrecemos llegar a un acuerdo que permita

si quiere hablemos de empleo hablemos de educación hablemos de salud hablemos de la naval

la pelota está en su tejado los que tienen que moverse son ustedes el gobierno porque son ustedes los que necesitan un socio y la responsabilidad de un fracaso sería suya

legebiltzarburu andrea señor martínez no sé si me ha escuchado usted en la intervención anterior en relación a lo de la naval en todo caso parece que en mi intervención en la respuesta usted tampoco ha escuchado lo que le he planteado propuestas

todas las partidas sociales van a tener una mayor asignación en dos mil diecinueve y el dilema es claro sin presupuesto las partidas se mantienen y con presupuesto

también en su mano está asignar más recursos como ya está previsto a la renta de garantía de ingresos proponemos un incremento del dos coma veinticinco por ciento el mismo incremento que las y los trabajadores públicos en su mano está también señor martínez asignar como está previsto

ayudas a la vivienda igualdad inversiones en educación y en salud

la agenda dos mil treinta plan de ayudas para las familias plan operativo contra la brecha salarial también en su mano está mejorar las condiciones como está previsto laborales

para garantizar subida salarial aportación a itzarri consolidar los acuerdos alcanzados en educación y en la carrera profesional

mire el marco económico de crecimiento y la evolución de la recaudación una ventana de oportunidad el gobierno plantea aprobar por primera vez un presupuesto que destine

del gasto social euskadi señor martínez es uno de los países con mayor equilibrio social de europa así lo confirma la tasa europea de riesgo de pobreza y índice que mide la desigualdad en la distribución de la renta

invierte proporcionalmente más en gasto social que el presupuesto de cualquier comunidad cogobernada por su partido señor martínez más que el presupuesto vigente en españa que ustedes han apoyado o apoyarán en su caso en la negociación

más que la resultante de las propuestas que ustedes han planteado de cara a esos presupuestos generales la pelota señor martínez está en su tejado en su tejado

para que euskadi siga siendo uno de los primeros países de europa en equilibrio social eskerrik asko

una buena noticia pronunciamiento que esta semana hemos recibido del tribunal constitucional porque

que los grupos parlamentarios que impulsamos la ley de vivienda durante la pasada legislatura no solo teníamos razón sino que más allá de eso sentábamos la base de lo que va a ser un

declararse como fundamental y que desde luego nos pone la punta de lanza en el desarrollo de nuevos derechos sociales en la sociedad vasca y a nivel del estado por tanto señor consejero creo que además de felicitarnos tiene por delante ahora sí un arduo trabajo en el desarrollo

ley en base a ese pronunciamiento del tribunal constitucional pero lógicamente más allá de lo que puede ser el felicitarnos por ese hecho tan significativo y por tener una ley que creo que nos pone en la vanguardia de la consecución de los derechos sociales de este país más allá del trabajo que tiene por delante y la consecución de un derecho también comporta una serie de obligaciones y en muchos casos para poder garantizar esos derechos y para que el buen uso

aquellas personas que tienen mayores dificultades para acceder a una vivienda digna y para poder iniciar un proyecto de vida cuando su situación

desigualdad de desventaja con respecto a otros ciudadanos y ciudadanas en este país como decía su departamento tiene también una importante

el estricto control para que las viviendas destinadas a esas personas que más lo necesitan tengan un uso adecuado por tanto en estos momentos en los que esa ley como decía al inicio de mi intervención comienza a tener un desarrollo un importante futuro por delante me gustaría saber qué está haciendo su departamento para garantizar que el uso de esas viviendas sociales sea el adecuado eskerrik asko

gracias señora presidenta señor andueza sencillamente comparto con usted la satisfacción por la sentencia del tribunal constitucional sobre la ley de vivienda

y en cuanto al motivo de su pregunta decirle que todos los derechos ciudadanos tienen un reverso en obligaciones y así el derecho a acceder a la vivienda lo establecimos en la ley de dos mil quince también tiene ese

para dar cumplimiento a ese derecho a la ciudadanía pero también tenemos que ser rigurosos a la hora de comprobar que tal derecho

y además se hace un uso adecuado de las viviendas y conforme a este criterio en esta legislatura nuestro departamento decidió entre otras medidas

desde el año dos mil cuatro de las viviendas de protección oficial

así a lo largo del diecisiete se inspeccionaron nueve mil quinientos dos viviendas

es decir el doce coma seis por ciento de ese parque de estas visitas de comprobación cuatro mil noventa y cinco fueron en bizkaia dos mil diez en gipuzkoa

y en lo que llevamos de este año hasta el pasado treinta de junio se habían hecho ya siete mil doscientos setenta y siete inspecciones de las cuales

han sido en bizkaia dos mil trescientos ochenta en gipuzkoa y dos mil doscientos cincuenta y tres en araba lo que es seguro que

en este año y medio y fruto de esta acción inspectora y de la comprobación de denuncias

de los cuales hasta el momento ciento ocho han devenido en sanciones el motivo más frecuente para sancionar es la no ocupación de la vivienda protegida que como sabe debe ser utilizada como residencia principal y permanente al adjudicatario por este motivo se han cerrado con sanción cuarenta y cinco expedientes

con veintiséis casos sancionados le sigue el alquiler no autorizado del piso con doce casos sancionados

que tienen una casuística diversa el importe de todas las sanciones impuestas en este periodo

una media de dos mil ochocientos ochenta y ocho euros por sanción es importante

que pone en valor la función social de la vivienda y especialmente de la protegida ha endurecido de forma muy considerable el importe de las sanciones de trescientos euros de multa a tres mil en el caso de las leves entre tres mil uno y veinte mil si son graves

un ejemplo en el caso de un expediente abierto a un propietario que puso en alquiler su vivienda

para alojamientos turísticos se ha impuesto una sanción leve

ocupación permanente de la vivienda y otra de carácter grave

cantidades que han sido ya abonadas nuestra intención es mantener la intensidad en el control de la utilización de parque de vivienda y por eso en próximas fechas el número de inspectores va a pasar de los ocho actuales

señor lehendakari señores consejeros señoras consejeras señorías muy buenos días quiero también comenzar saludando a los trabajadores de la naval que acuden hoy al pleno y con los que queremos trasladar un mensaje de ánimo circunstancia difícil futuro incierto

que la paciencia se le está agotando decía el señor ortuzar la paciencia de usted y la paciencia de su gobierno y es verdad como decía cervantes

las ansias crecen las esperanzas menguan al pnv se le acaba la paciencia

que su idilio con el señor pedro sánchez haya durado tan poco porque los amores de verano ya se sabe que son cosa fugaz se diluyen con las lluvias del otoño

tampoco era un idilio en el que ustedes anduvieran demasiado convencidos pero

cuál es la naturaleza de los compromisos que se han incumplido dice se incumplen compromisos

qué compromisos concretos tienen ustedes con el gobierno de pedro sánchez qué compromisos cerraron cuándo cerraron esos compromisos son compromisos adquiridos previamente

son compromisos concretos que usted recibió o qué palabra o qué promesa recibió usted cuando fue a visitar al señor pedro sánchez por qué esta cámara no conoce

qué es eso de que hay treinta transferencias que el señor sánchez estaba ya dispuesto a llevar adelante por qué dice el señor erkoreka que todo va muy bien y en su partido dicen que todo va fatal

cuáles son los compromisos puntuales concretos que tiene usted con ese gobierno para que todos sepamos cuál va a ser el éxito o no

en madrid más allá de que conocemos algunos compromisos

y con el partido popular que el partido socialista tampoco es capaz de llevar adelante así que si es tan amable de explicarnos y aclarar exactamente cuál es el compromiso

señor alonso para intentar desenredarle a usted

creo que es pertinente recordar que si no me confundo estamos hablando principalmente de los compromisos que acordó

del partido popular no me equivoco con el grupo nacionalista en el congreso en la tramitación de los presupuestos generales y que el gobierno socialista ha asumido

mire el compromiso que exige el gobierno vasco el gobierno el gobierno y el gobierno no ha hablado de paciencia el compromiso que exige el gobierno vasco al igual que este parlamento que este parlamento es el cumplimiento íntegro del estatuto

ese que el día del debate de política general usted dijo que no estaba incumplido un compromiso con la sociedad vasca que el actual gobierno

este parlamento ha reclamado al gobierno español un plan y un calendario de trabajo para la materialización de las transferencias pendientes

sin el voto favorable de su partido señor alonso mire yo creo que con voluntad política este compromiso puede ser cumplido estoy convencido y de hecho las últimas dieciséis transferencias las ultimas dieciséis transferencias

y era yo presidente del partido nacionalista vasco quienes negociaron también con

con el gobierno del partido socialista obrero español y el resultado ha sido positivo para ambas partes se ha mejorado el servicio a la ciudadanía nadie ha perdido nada la clave es la voluntad política algo que no se dio con el gobierno rajoy quien durante siete largos años no aprobó ni una sola transferencia ni siquiera

dado el cambio de su política de alianzas en madrid la pregunta es si alguna vez a usted el presidente del gobierno señor sánchez le ha

a abordar esas transferencias que las va a hacer le ha puesto un plazo le ha dado un calendario cuál es

porque de lo contrario cómo se puede hablar de compromisos incumplidos ha dado su palabra sánchez de que iba a hacer algo de eso eso condiciona la relación suya política en madrid

no parece que ustedes hayan hecho muy buen negocio más bien parece que ustedes han hecho un negocio bastante mediocre

es decir han apostado por una situación de inestabilidad política de incertidumbre es verdad que esta mañana a usted la ha salido un novio aquí el señor martínez quiere negociar con usted no le he visto a usted muy receptivo pero ellos parecen que quieren

bueno en fin yo creo que con esos nuevos noviazgos este otoño no va a ir usted muy lejos pero debería aclarar si el señor sánchez se ha comprometido exactamente algo porque de lo contrario pues usted se ha quedado en una situación en la que no tiene mayoría en esta cámara para impulsar sus políticas

ha hecho muy mal negocio con este cambio que han llevado adelante en madrid eskerrik asko alonso jauna erantzuteko lehendakari jauna zurea da hitza

usted ha hecho un mal negocio usted el voto

del gobierno mire trasferencias con el partido popular cero

sí pero no obstante tampoco quiero desdeñar los avances con el gobierno de pedro sánchez primero ha mantenido los compromisos de inversiones del presupuesto y le recuerdo que su partido

trató de auto enmendar sus propios presupuestos en el senado

segundo ha remitido la propuesta inicial para el traspaso de dos líneas ferroviarias y el tramo de la a uno negociación

tercero hemos acordado la retirada del recurso a la denominada ley de abusos policiales aprobada por esta cámara y recurrida por el gobierno del partido popular cuarto se ha dado un impulso a las inversiones en el nudo de bergara de la y vasca dice que hemos hecho un mal negocio

no busque culpables en el exterior la responsabilidad de que el partido popular no esté en el gobierno es del partido popular es del partido popular habla usted de recuperar puentes para negociar los presupuestos mire nuestra mano también está tendida a ustedes

asentando los pilares y acercando posturas hasta alcanzar un encuentro

lo que sufrimos en la calle mayor de hondarribia fue una agresión y fue organizada repito una agresión organizada contra el derecho fundamental que tenemos las mujeres a participar

y esta agresión organizada ha subido de intensidad este año y por qué pues porque los y las atacantes

saben que la compañía jaizkibel no tiene el respaldo de las principales

quienes atacan se sienten cargados y cargadas de razón con la cobertura de un gran paraguas institucional el del ayuntamiento de hondarribia el de la diputación de gipuzkoa y en gran medida

es el que aviva el enfrentamiento y no habrá solución posible hasta que la discriminación contra las mujeres reciba

y el alarde igualitario reciba el apoyo institucional que se le debe he dicho que fue una agresión organizada pero también tengo que subrayar azpimarratu behar dut minoritarioa izan zela es una minoría concentrada en la calle

de forma premeditada y ordenada pero fuera de esa calle estrecha esa en la que no hay más distancia que la que separa su escaño del mío

en pie de igualdad y así lo hizo en las demás horas del ocho de septiembre

en igualdad aunque haya una minoría que sigue queriendo enseñar lo contrario no infravaloremos su agresión pero no magnifiquemos su representatividad

en todo caso creo que no debemos minimizar el conflicto las heridas en el pueblo son profundas

y especialmente entre las chicas y chicos más jóvenes que participan en el alarde igualitario y por eso creemos que esta situación requiere de una intervención pública no vale mirar a otro lado y luego lamentar lo ocurrido gero eta zailagoa da gure ustez bi mila hemezortzian ulertaraztea nola ez den posible

este año mi convencimiento es que estas actitudes los gritos e insultos que la compañía recibió no son compartidas por la mayoría de la ciudadanía

de la ciudadanía de hondarribia cansada de trasladar esta imagen en torno al alarde quiero por lo tanto en primer lugar mostrar mi apoyo a las personas integrantes de la compañía y recordar que el apoyo de este gobierno al alarde igualitario a través de la presencia de la dirección de emakunde en el mismo es constante e inequívoco honekin batera

el nivel de concienciación y la sensibilización de la ciudadanía en torno a la igualdad en general

un nivel de exigencia elevado con respecto a las políticas de las instituciones públicas en esta materia un nivel de exigencia y una demanda ciudadana a la que debemos ser capaces de ser respuesta zuk zer egiteko prest gauden galdetzen didazu

creo sinceramente que la solución a este conflicto que se vive desde hace más de veinte años como usted ha recordado vendrá de la mano del diálogo constructivo y sincero como primer paso para posibilitar vías para el entendimiento

un papel activo en la búsqueda de soluciones y desde el gobierno vasco estamos tratando de hacerlo pero necesitamos una actitud constructiva por parte sobre todo

en este caso estamos hablando de hondarribia lo digo porque otras muchas localidades de nuestro país han dado este paso

y contando con la implicación de la ciudadanía han logrado enriquecer sus tradiciones garantizando la participación igualitaria en distintos actos festivos en conmemoraciones

creo también que las tradiciones son un elemento clave de la cohesión social de nuestros pueblos pero nacieron las tradiciones en un contexto o en contextos determinados y su adaptación a los nuevos tiempos

tal y como expresé en esta cámara la solución duradera no vendrá por imposición sino a través de diálogo y el consenso entre las partes implicadas

muy especialmente cuando todas las partes en el municipio comparten la idea de que la solución tiene que partir desde su propio seno

tenemos que implicarnos también todas las instituciones y nosotros seguiremos participando en la comisión interinstitucional liderada por la diputación foral de gipuzkoa en la que estamos presentes todas las instituciones concernidas ayuntamiento de la localidad de hondarribia gobierno a través de emakunde y ararteko considero

de forma que podamos avanzar en la búsqueda de una solución que normalice la convivencia y creo que este es el deseo común que todas y todos compartimos

tal y como señala el tribunal constitucional que permita vincular u obligar al estado a convocar

sobre titularidad de las competencias egia izateko hau irakurri nebanean era kolokial batean esateko

hablando qué es que estamos hablando por teléfono y entonces el diálogo nos parece suficiente porque nos llamamos y nos cogen el teléfono algo más que hablar por teléfono tendremos que hacer

y el problema no tiene que ver tanto con quién está en el gobierno

está en cada momento porque parece que esté el pp esté el partido socialista pase lo que pase sigue pasando lo mismo porque el problema creo yo y así se lo digo es estructural el gobierno de españa esté quien esté no tiene de momento ninguna intención de sentarse para ceder algo de su poder que es de lo que estamos hablando cuando estamos hablando de transferencias y eso va en el ser de todos los gobiernos que según llegan

de esas actitudes y de esa forma de ser y siguen haciendo lo mismo

y aunque acuerden con el gobierno que una de sus prioridades es conseguir todas las transferencias

kudeatzeko bi urteetan zehar va a tomar medidas efectivas este gobierno para aclarar de una vez

y qué consecuencias tuvo para la administración y cómo no para la sociedad va a seguir rezando este gobierno para que la sentencias sean favorables y así evitar mover ficha evitando también

esto se lo dije ya en una iniciativa que planteo usted el año pasado

de reintegro por valor de tres coma dos millónes de euros contra la citada empresa para recuperar las subvenciones concedidas en su día y no justificadas ni tampoco retornadas y además ha comparecido en el procedimiento concursal en la jurisdicción mercantil correspondiente reclamando todas las cantidades adeudadas que se encuentran sin justificar no a usted le parece que es una actitud

nada menos que de tres coma dos millónes de euros sería una manera muy singular de amparar y de respaldar una gestión me habla usted efectivamente de la sentencia recientemente dictada por la audiencia provincial de bizkaia que usted al parecer comparte

que hablábamos también de la sentencia dictada en la primera instancia y usted

y como todavía el procedimiento no ha concluido y cabe una tercera instancia a saber lo que dentro de uno o dos años sí se activa la tercera instancia me pueda a decir en relación con la sentencia que hipotéticamente dicte el tribunal supremo en esta materia

ahora exactamente lo que dije el año pasado lo mismo y seguro

y leo del diario de sesiones yo no voy a valorar la sentencia no la voy a alabar ni la voy a aplaudir

como entonces y como también en el futuro el gobierno va a continuar personado en ese procedimiento concursal en defensa de las subvenciones concedidas en su día y ni justificadas

bai egun on berriro yo respeto las decisiones judiciales ni las comparto ni las tengo que dejar de compartir usted nos dijo en marzo tras la anterior sentencia que nos situábamos ante un nuevo escenario y efectivamente usted entonces acertó hoy estamos ante otro escenario eso sí bastante peor y cada vez un poco peor y nos encontramos con una sentencia que enmienda la totalidad aquella eso yo creo que eso no pone nadie en duda era cierto que era recurrible y de hecho así ha sido cuántas sentencias cuántos recursos cuántos cartuchos se tienen que quemar

qué tiene que pasar para que este gobierno defienda los intereses el dinero público de la ciudadanía acaso en carranza la administración también creo ciertas operativas que al final no se cumplieron o es que simplemente vendieron humo

acaso ciertas personas con mucho poder político en el gobierno crearon y creyeron incluso

tanto cuesta decir alto y claro que se hizo algo mal qué algo se hizo muy mal y que su gobierno está pasando el tiempo está esperando que esto pase y está esperando que esto deje de oler a purín euskal herria bildu tiene

como grupo en una actitud más que propositiva con un punto de preocupación eso es verdad desde luego no sabemos el alcance de los casos que ha habido pero sí sabemos que se necesitan herramientas para una regeneración democrática para evitar casos como el de carranza y para evitar casos otros que se vuelvan a producir

proponemos quitar aforamientos a altos cargos propuestas y medidas para que casos como este no se puedan dar y en el caso de que se den buscar responsabilidades porque es nuestro trabajo es el trabajo del gobierno también

está inhabilitado para administrar empresas durante dos años pero bueno sigue firmando contratos

como representante de la empresa que construye la incineradora en zubieta otra gran infraestructura que más allá de estar en duda nos traerá grandes momentos lotsagarria da martin ascacibar zubietako erraustegiaren proiektua

pertsonentzat posiciones de forma transparente es

para evitar que casos como el de carranza se vuelvan a dar para que las sospechas no tengan cabida en esta cámara ni en nuestro país incluso

reclamen activamente la responsabilidad derivada de la culpabilidad en el caso

sino estarán defendiendo intereses privados intereses incluso se puede decir que delictivos de ciertas personas

señora lópez de arroyabe en este totum revolutum de la segunda intervención

lo del aforamiento viene de allí es un legado importante para ustedes muy significativo hasta casos como el de zubieta que afectan a una persona que no es cargo público del gobierno desde hace ya

es que la representación letrada del gobierno en ese procedimiento concursal está siendo tan riguroso y tan

en todos los procedimientos concursales en los que comparece el gobierno como acreedor exactamente igual de riguroso y de dirigente

durante los años de la crisis además no son números pocos precisamente los procedimientos concursales en los que participa el gobierno entre el año dos mil doce y el año dos mil quince

cuarenta procedimientos de esa naturaleza en los que el gobierno actúa como creador nunca nunca en ningún caso en esos procedimientos ha actuado al margen de lo que le corresponde y fíjese para en este caso si quiere usted un indicador que evalúe cuál ha sido el criterio y la actitud del gobierno es que

recurrir la primera resolución en la primera instancia hemos sacado exactamente igual que la fiscalía exactamente igual que la fiscalía no sé si usted considera que la fiscalía es también en este caso no lo sé

en lo que le puedo decir es que el gobierno sigue siendo riguroso sigue siendo dirigente en el procedimiento y está presente en el procedimiento concursal hasta el final exigiendo esos millónes de euros que le deben y en el penal efectivamente sigue todavía sigue

es saber de su boca qué intenciones tiene el gobierno para facilitar apoyar o impulsar que la naval se convierta en una empresa de capital público o con participación pública nuestro grupo entiende que en la fase de liquidación en la que vamos a entrar ya el rescate público es la única salida y entiéndame el recate público como la necesidad

en el que está usted de su gobierno fuera la que mantenía el gobierno vasco en el dos mil cuatro

el gobierno vasco del señor ibarretxe de su partido firmó una declaración conjunta con el comité de empresa de la naval en la que decía en el punto tres estimamos que la garantía del mantenimiento en la actividad y el empleo en la naval de sestao

pasa necesariamente por su mantenimiento en el grupo público estatal dado que en caso contrario quedaría sometida a un proceso de quiebra condenada a su liquidación y en definitiva al cese de su actividad por qué me gusta este posicionamiento del gobierno porque acertó acertó en su diagnóstico la privatización de la naval le ha llevado a la situación en la que se encuentra ahora mismo

sevilla manises gijón y sestao solo queda abierto ya la naval y además todos los acuerdos que firmó el gobierno central con los sindicatos fueron incumplidos entre ellos la venta conjunta de estos astilleros por la existencia la elaboración de un plan industrial

y sin embargo consideramos desde nuestro grupo que no lo es el que han hecho ustedes en los últimos años a día de hoy ustedes ya solo tienen una hoja de ruta oficial con la naval que se termine la draga y dos buscar un inversor incluso el delegado del gobierno el señor loza se ha atrevido a ponerle apelativo un inversor serio ha dicho y lo que décimos en nuestro grupo es para terminar la draga el armador

nadie termina un barco en un astillero que está en liquidación y que no tiene dirección

es un inversor pero no va a haber un inversor serio como diría el señor loza nunca habrá un inversor serio que llegue a un astillero al que las instituciones del país

le han dado la espalda por lo tanto la única garantía la única garantía que puede darse a día de hoy es que

cambien su actitud cambien su actitud y sus declaraciones porque hace un año el lehendakari nos hablaba de que las empresas como la naval se las y nosotros dijimos hace un año que lo único que hacia el lehendakari y el gobierno era acompañarlas

y eso es lo que ha hecho este gobierno con la naval en el último año acompañarla hasta el precipicio y ahora está en el precipicio como ha dicho el señor casanova le queda

es necesario por lo tanto desde el punto de vista de nuestro grupo un compromiso institucional firme decidido e inequívoco esa es la única garantía que estará buscando un nuevo inversor y un armador con el señor van oord beraz hori da gakoa

la naval señora tapia es una empresa viable es una astillero viable lo saben ustedes

casi cincuenta millónes de euros solo ha empezado a perder dinero cuando la mala gestión de su equipo directivo ha influido en ello además

que establecieron los bancos para garantizarse que se pueda construir la draga por lo tanto es viable

y además como ha dicho también el señor casanova tiene el nivel tecnológico y el saber hacer suficiente como para seguir abierto y seguir funcionando y seguir siendo el astillero de referencia que necesita este país y aprovecho ahora a saludar

al comité de empresa y a la gente que ha venido de la naval porque a día de hoy

con esa continuación están siendo ellos desde luego el gobierno no ellos son quienes están defendiendo que incluso con un solo barco este astillero puede mantener entre mil quinientos y dos mil puestos de trabajo y puede mantener sobre todo

auxiliar que ello acarrea porque el sector naval es un sector

es un sector estratégico y así lo están considerando otros gobiernos otros gobiernos que no son el gobierno vasco ustedes han dicho durante este año yo diría que más que existen obstáculos legales a la participación pública y eso no es cierto no es cierto

no hay ningún obstáculo legal a la participación pública

en dos mil once cuando el gobierno del señor lópez decidió también tomar una participación en la naval

el entonces vicepresidente de la comisión europea y responsable de la competencia joaquín almunia dijo y lo voy a

para que lo puedan ver así de claro que no establecemos en la comisión diferencias sobre la procedencia de la inversión sea pública o privada esto es el gobierno vasco podrá invertir en la naval si lo hace en las mismas condiciones de riesgo precio y remuneración que lo haría cualquier otro inversor privado esto es lo que puede hacer en la fase de liquidación ir como cualquier otra empresa a hacerse con los activos pero además la propia unión europea

que la participación de las administraciones públicas en empresas solo se considerará ayuda de estado cuando se logre favorecer así a determinadas empresas o sectores que falseen o amenacen falsear la competencia y esto no es el caso

no se falsea ni se amenaza a la competencia simplemente se hace una empresa sea pública o privada con los activos en este caso de un astillero en liquidación y así lo ha entendido el gobierno francés cuando ha nacionalizado esto sí nacionalizado

tengo que decir para que todos ustedes lo sepan que este astillero este astillero que era propiedad de una multinacional coreana que entró en quiebra entró en quiebra en mayo de dos mil diecisiete

y trabajo para quinientos subcontratistas el gobierno francés decidió

el gobierno francés del señor macron neoliberal neoliberal decidió nacionalizarlo pagando ochenta millónes de euros bien

hubo europarlamentarios algunos de ellos españoles que preguntaron a la comisaria

a ver si eso constituían ayudas de estado y dijo textualmente en su comparecencia

las normas del tratado sobre la neutralidad de la propiedad pública o privada permiten la propiedad y el control en última instancia

en liquidación lo dice la comisaria de la competencia en liquidación en liquidación cualquier

sin que ello sea objeto de examen ni siquiera de examen a la luz de la normativa sobre ayudas estatales es decir

sin que ello constituya ni siquiera objeto de procedimiento por parte de la comisión europea

puesto que la adquisición de acciones existentes en poder de un tercero no aporta en sentido estricto nuevos recursos del estado a la empresa por lo tanto

participar públicamente en la naval yo lo que le pido ahora es un compromiso público les pido que salgan de la trinchera de las excusas de la barricada del conformismo y que cambien aquí hoy y ahora su actitud y nos digan con claridad si se comprometen o no
a rescatar parcial o totalmente a la naval solos eskerrik asko becerra jauna tapia andrea

la situación de la naval no solo nos preocupa sino que nos ha ocupado nos ocupa ha ocupado a gobiernos anteriores y ocupa pero no ocupa solamente para mirarlo nos ha llevado mucho tiempo mucho esfuerzo tratar de evitar llegar a concurso y a partir de que entró en concurso

nadie lo puede decir vamos a ser entonces claros con las cosas y cómo las contamos reconocemos que la liquidación el cierre de una empresa es una situación traumática y en este caso situación traumática para todos y cada uno de los trabajadores y sus familias pero eso no nos debe llevar a tergiversar la realidad y mucho menos a hacer declaraciones públicas que no tienen ningún sentido

en el momento de presentar esta interpelación hablaba de una desindustrialización vamos a dejar las cosas claras la crisis ha pegado muy fuerte y en aquel momento

no existe desindustrialización todo lo contrario el índice de producción industrial sube y la industrialización sube luego vamos a ser claros es verdad en ezkerraldea que está en dificultades y usted sabe perfectamente que como consecuencia

de una actuación de este parlamento además estamos trabajando diputaciones forales ayuntamientos gobierno vasco

como en la zona de oarsoaldea con un plan de choque y un plan a largo plazo lo sabe usted y lo vamos a presentar en este parlamento luego ni olvidados

no por ello la situación de la naval es menos desgarradora en estos momentos y desde luego la situación del sector naval en euskadi se ve afectado por la situación de la naval

usted perfectamente la legislatura anterior además nos vimos obligados a trabajar con todo el sector a constituir una mesa de trabajo porque nos encontrábamos en

y por ello además el sector ha mejorado se ha diversificado ha trabajado en el ámbito internacional

es un sector que ha mejorado acompañado también y usted utilice la palabra acompañar como usted le dé la gana pero el acompañamiento supone además muchas cosas de la mano del gobierno

positivo ahora bien vamos a centrarnos en el caso de la naval y vamos a contar toda la historia señor becerra toda no solamente la última parte porque conviene hacerlo conviene hacerlo para clarificar la situación en primer lugar

mil novecientos noventa y siete la comisión y el consejo de la unión europea aprueba una ayuda de reestructuración de los astilleros estatales públicos

euros bajo la condición de que no se otorgase otra ayuda para ese objetivo luego es posible es cierto que es posible dar ayudas en reestructuración una vez una única vez y se dio como consecuencia de eso en el año dos mil entre noventa y nueve y dos mil la sepi vuelve a dar ayudas

porque se dieron en forma de aportación de capital y de prestamos por valor de quinientos millónes de euros que la unión europea consideró como ayudas de estado

era la segunda vez y por tanto obligó a su recuperación obligó a su recuperación y todo ello a que se tomara la decisión de privatizar únicamente los astilleros civiles y ahí es donde en el año dos mil cuatro el gobierno del lehendakari ibarretxe dice

con esa privatización por qué se privatiza únicamente los astilleros civiles y se mantienen los militares hay que tener en cuenta de dónde partíamos y evidentemente en ese momento se acertó las cosas no se hicieron bien pero en este momento estamos sujetos a una nueva normativa una nueva directriz europea que sin duda usted conoce la dos mil catorce

doscientos cuarenta y nueve barra uno de la comisión europea que dice además

que una vez otorgadas esas ayudas es decir la del año noventa y siete la empresa de nueva creación que ha surgido de la liquidación de la empresa anterior o de la absorción de sus activos es decir cnn la naval no puede ser susceptible de esas ayudas

no es que no sean posibles son posibles una vez ya se recibieron y no ha sido posible utilizarlas en este momento ahora bien nos encontramos en este momento en situación de liquidación

medidas de apoyo a una empresa en una situación de liquidación cuando exista un inversor siempre acompañado de un inversor y voy a ir a una de las medidas concretas

esa es la regla que nos permite la directriz europea y nos dice que en primer lugar facilitamos o se facilita la

la coinversión de una entidad o varias entidades públicas siempre y cuando participe en un porcentaje igual o inferior al realizado por el inversor privado luego publificación es imposible

tener más del cincuenta por ciento ahora bien inversión pública y vamos a ser claros y vamos a utilizar las palabras bien porque si no nos abren un expediente informativo y no nos conviene

inversión pública es posible en condiciones de mercado y nos llevaría a inversión en forma de aportación y además en capacidad de actuación

me refiero a sus palabras pero no solo eso es posible una vez exista un inversor privado y se pueda salvar esa empresa además

la subvención prevista a intereses por parte del real decreto ochocientos setenta y cuatro barra dos mil diecisiete

se puede acudir a en este caso podría acudir incluso a ayudas regionales puesto que está en zona desfavorecida en sestao

una vez exista un inversor privado al que podamos acompañar y además usted lo decía en el momento en el que el señor lópez era lehendakari también se intentó

adoptaron un acuerdo de tomar una participación de cinco millónes de euros el inversor privado los accionistas privados de la naval no lo quisieron

necesitamos que quiera nuestro acompañamiento por tanto nuestro compromiso sí pero tienen que darse toda esa serie de circunstancias vamos a aclarar más aspectos me hablaba usted de otros astilleros otros países que lo han podido hacer y además de los que usted ha contado hay otros dos

y el caso portugués y le puedo hablar de los tres y en el caso croata

en el estado español en el año noventa y siete no ha sido posible recuperar los avales eran en forma de avales noventa y siete millónes de euros y en este momento el astillero está en liquidación y el estado no ha podido recuperar sus avales

también el gobierno portugués decidió dotar de doscientos millónes de euros de ayudas a un astillero al astillero de portugal y en este momento la unión europea

en el caso francés en el caso francés partíamos de la situación de que el gobierno ya era accionista ya era accionista de alrededor de un treinta por ciento treinta treinta y cinco por ciento

y toma esa participación a uno de los accionistas que se encuentra en insolvencia de forma temporal transitoria puesto que estaba negociando

y se ha hecho de hecho con el cincuenta y uno por ciento del astillero transitorio por tanto mientras se producía esa negociación y además en estos momentos

donde además algo de lo que no habla nadie y también es importante los propios trabajadores también son partícipes de esa empresa y en estos momentos por cierto

esa ayuda transitoria luego vamos a ser cuidadosos con las palabras que utilizamos rescate no porque no es posible participación pública sí en condiciones de mercado acordándolo en función de lo que nos permite la unión europea luego
vamos a contarlo todo y vamos tratar de ser lo más exquisitos posible en las formas en que lo utilizamos eskerrik asko eskerrik asko

señora tapia a veces ser exquisitos con las palabras

determinados extremos a usted no le gusta la palabra publificación ni le gusta la palabra rescate pero sí le gusta la palabra acompañamiento que no significa nada

efectivamente acompañamiento significa coinversión pero esto no le hemos oído a ustedes ustedes cuando han hablado de acompañamiento hasta ahora han hablado

el seis de octubre de dos mil diecisiete me dice hay inversores igual usted no los ve pero los hay y dónde están un año después dónde están los inversores no los hemos visto ni yo ni nadie ni el comité de empresa ni nadie no los ha visto nadie entonces

vamos a llamarle participación pública pero usted reconozca

que es posible en la fase de liquidación lo he dicho al principio en la fase de liquidación

es posible bien si ya estamos de acuerdo en eso lo que no ayuda

las suyas propias diciendo que no no y no se puede participar en la naval

efectivamente el gobierno francés participó temporal y transitoriamente claro pero participó participó

inversor privado que se vaya a meter en un astillero en liquidación a comprar unos activos que valen cuatro euros porque a día de hoy

teniendo en cuenta que todas las instituciones del país léase diputación que está

que por supuesto tampoco qué inversor va a venir a comprar la naval nadie

nadie va a venir si no hay un compromiso de la administración yo lo que le estoy pidiendo es ustedes como parte de la administración también le he recordado que el gobierno vasco no es el único

asuman un compromiso de participación pública y entonces nos olvidamos de la cuestión terminológica y nos vamos

que es que no podemos dejar a un astillero como la naval que efectivamente claro el sector naval está mejorando pero es que la naval no es un astillero cualquiera

la naval hace barcos de tecnología puntera de construcción civil y no hay muchos astilleros en el mundo que hagan eso perder la naval no es perder un astillero

el astillero y entonces yo creo que tenemos margen para encontrarnos efectivamente el gobierno francés bueno iba a decir rescató

hablar de nacionalización pero es lo que hizo nacionalizar eh no le gustaba porque evidentemente a él terminológicamente la cuestión tampoco le iba mucho neoliberal como era él pero puso el dinero y se quedó con el cincuenta por ciento de las acciones y una acción durante doce años

evidentemente en el accionariado en el consejo de administración ahora mismo de stx france hay cuatro miembros designados

dos designados por el estado francés uno por un astillero francés privado y otro designado por los empleados y empleadas tiene usted razón tiene usted razón las empresas locales tienen un tres coma veintiséis por ciento del accionariado y los empleados y empleadas tienen un dos coma cuarenta por ciento es que eso no es descartable no es descartable que parte de la

se haga cargo de la naval lo que no se puede es dejar en manos de propietarios como los que hemos tenido a los que ustedes tampoco les han afeado la conducta quienes han llevado a día de hoy a la ruina a la naval

entonces yo le digo si ustedes comprometen la participación pública tenemos margen para que haya aquí un acuerdo de país sobre la naval pero si siguen diciendo que no es posible y que la unión europea no lo permite pues entonces no la tendremos yo no he hablado en ningún momento de avales yo no he hablado de inyecciones de capital ni de otros fondos de ayudas para innovación que es lo que le dijo en su momento la comisión europea por carta

hemos tenido conocimiento por informaciones publicadas en la prensa

no nosotros pedimos que se adquiera una participación en la fase

becerra parece que no me escucha pero tampoco escucha al lehendakari porque ya lo dijo no hoy que lo ha reiterado

dijo una vez que la empresa salga de la crisis valoraremos nuestra participación y de ahí vino esa carta a la que usted hace referencia que en una situación de crisis porque ya se encontraba en concurso

no puede otorgar a una empresa en crisis ayudas ni de investigación ni de avales ni de otra circunstancia por eso nos pedía explicaciones pero yo le he dicho

un inversor privado al que podemos acompañar hasta el cincuenta por ciento y acompañar en este caso es coinvertir

hasta el cincuenta por ciento como máximo en ese momento además se puede acudir a otro tipo de ayudas porque se está constituyendo una empresa nueva

no hasta ahora no hasta ahora y eso es así y no se ha podido hacer y se lo he explicado por qué por qué ni siquiera hemos podido utilizar ayudas a reestructuración porque ya se dieron una vez luego vamos a centrarnos en lo que estamos diciendo

si el gobierno no participa pues cuando se privatizaron aquellos astilleros

en todos no vamos a valorar y usted me dice además que no les he afeado su conducta bueno

todo lo que hemos trabajado con ellos pero estamos en la circunstancia que estamos y me dice que es imposible que eso sea así eso es posible y ha habido inversores que han visitado y lo sabe el comité de empresa lo sabe porque los han visto otra cosa es que no se ha materializado ninguna propuesta

ahora pueden aparecer porque ahora se aclara mucho más para ellos la situación

buques de una característica especial tampoco le voy a permitir que diga que los buques de pesca los buques que en este momento se han construido también para atención a la plataforma offshore uno no son tecnológicos y son de segundo nivel

tienen una forma de actuar los de pesca que no existen en el mundo los atuneros congeladores que se hacen en euskadi no se utilizan en otro lugar del mundo no se hacen de la misma forma no utilizan la misma tecnología no utilizan formas de pesca sostenibles

cada uno tiene su mercado cada uno trabaja en un sector diferente en un nicho diferente dentro del sector naval todos igual de tecnológicos y bien preparados y por favor vamos a ser un poco coherentes en esa situación a partir de aquí

podemos actuar podemos acompañar

trabajar con la parte financiera con la banca que ha sido imprescindible para llegar hasta aquí en

rescate cuidado rescate cuidado y las palabras también

y vamos a hacer todo lo que podamos hacer de la forma que podamos hacer y me decía usted quiénes eran los partícipes en ese consejo de administración

porque también dice allá donde dice que la entidad pública deberá participar con un porcentaje igual o inferior al asumido por el inversor privado dice

en la nueva empresa deberán ser proporcionales a su participación en el capital social es decir

el consejo de administración exactamente igual que lo hace un privado evidente eso no es novedoso eso lo hacemos en cualquier otra empresa en la que también participamos que no es la primera ni va a ser la última espero luego vamos a ser cuidadosos nuestro compromiso existe pero

cuando exista uno o varios inversores privados y siempre que ellos nos quieran a partir de ahí adelante vamos a trabajar para conseguir
siga siendo un éxito como lo ha sido hasta ahora eskerrik asko tapia

buenos días gracias señora presidenta señora consejera consejeros señorías el diesel tiene los días contados en españa así aterrizó y se estrenó la señora ministra de transición ecológica del gobierno de españa estigmatizando a los vehículos de gasoil

a todo un sector argumentando que

impacto ambiental y sobre todo por las partículas contaminantes que respiramos en las ciudades derivadas de estos motores apelando como no a los efectos que esto puede provocar en la salud de los ciudadanos argumento simple y de trazo grueso hecho con el ánimo de alarmar y confundir más que el de aclarar a las declaraciones de la señora ministra de transición ecológica

señor sánchez anunciando que quizá podría aprobar un impuesto del quince por ciento

es un globo sonda y siguió la titular de hacienda diciendo que estaba trabajando para un impuesto sin afán

como ven el festival de la confusión todo ello sin un informe o estudio que acredite que con este impuesto se van a mejorar

no contamina más que la gasolina el diesel es el combustible más eficiente y con menores emisiones de ce o dos si comparamos

son los vehículos de más de diez años los vehículos diesel nuevos presentan un consumo veinticinco por ciento inferior y emisiones de ce o dos por km por ciento inferiores a los vehículos de gasolina los vehículos diesel nuevos y los de gasolina producen emisiones contaminantes

si hablamos de vehículos antiguos de más de diez años como les decía independientemente de que sean diesel o gasolina los niveles de emisiones de ce o dos

por eso para reducir niveles de contaminación la solución pasa por retirar estos vehículos viejos e ineficientes

los nuevos vehículos diesel emiten un ochenta y cuatro por ciento menos de emisiones

quince años por eso señora consejera el gobierno del señor rajoy en los presupuestos generales del gobierno de españa que ustedes aprobaron su partido ustedes también estarían a favor supongo aprobaron una partida de cincuenta millónes de euros para

pero qué pasa que el señor lehendakari no sabía el presupuesto

ese que votaron ustedes a favor no se está cumpliendo y esta partida no se está utilizando

ahí están anclados en el mapa como decía el señor imaz esta semana en un artículo muy interesante si fuesemos capaces de renovar el parque automovilístico actual

sería pasado porque la contaminación se reduciría drásticamente esta es la línea un programa de renovación del parque automovilístico

y también la de mayor progresividad social los colectivos con vehículos diesel antiguos coinciden en una mayoría de los casos con los sectores de menor renta que hoy gracias al gobierno del señor sánchez y su incontinencia verbal

su vehículo no vale nada pasando o pensando en la renovación del parque automovilístico como le decía tenemos los presupuestos que ustedes aprobaron unos presupuestos que

sostenibles esta es la solución y fijémonos en lo que por ejemplo esta semana el gobierno alemán ha acordado la renovación de los coches diesel antiguos mediante incentivos nada de impuestos la movilidad sostenible se consigue renovando los vehículos antiguos contaminante en ningún caso

a los vascos con más impuestos y señora consejera no tiene nada que decir a toda esta situación ni una palabra en todo este tiempo

certidumbre y yo me pregunto pero si ya lo deben de saber para tener certidumbre hay que elegir un buen compañero de viaje

tenían los presupuestos tenían al señor rajoy tenían la partida y lo aparcaron

el peor compañero de viaje su ansia nacionalista les ha podido y lo cambiaron por todo por la inoperancia por la irresponsabilidad por el desgobierno

gobernar no es un simulacro gobernar exige responsabilidad y cuando no se tiene responsabilidad cuando no se tiene conciencia de estado se genera incertidumbre eso que decía

que frena la economía y que favorece el desempleo ustedes

ustedes fueron pieza clave para este esperpento que cada día va

ustedes son corresponsables de esta situación y ahora señora consejera de desarrollo económico

y en el país vasco ante el desafortunado anuncio como le decía que el diesel tiene los días contados españa es el segundo fabricante europeo de coches después de alemania

y casi dos millónes serían los empleos de componentes de automoción en riesgo en el país vasco vitoria

es la mayor perjudicada afecta

empleos del sector de la automoción supone un cuarenta y seis por ciento de las ventas al exterior en álava

y usted señora consejera ni una palabra el lehendakari tampoco nadie de su gobierno una palabra

un catorce coma dos por ciento de las exportaciones de la comunidad autónoma la planta de mercedes es la mayor factoría del país vasco cinco mil seiscientos trabajadores y ante la actual inestabilidad

en torno a los vehículos diesel las inoportunas declaraciones de los miembros del gobierno las ventas

se han desplomado un trece por ciento en el país vasco un diecisiete por ciento en el resto de españa esta situación está teniendo

pero no se han preocupado o por lo menos públicamente no han manifestado

a la anunciada suspensión de actividad en los meses de octubre durante cinco días se le suma el parón de cinco días entre noviembre y diciembre además tiene previsto eliminar el turno de noche durante un mes

el tercer turno que están en riesgo estos paros se acuerdan o son consecuencia del descenso de ventas y de la caída de la previsión de fabricación de vehículos

hace quince días hablamos de un ocho por ciento en la caída de producción en esta planta el ochenta y cinco por ciento de los vehículos que salen de las líneas de montaje

existe el riesgo de que este problema en mercedes debido a la crisis pueda dejar de ser algo coyuntural para convertirse en estructural

ayer venía en prensa señora consejera si españa tiene este gobierno desnortado con anuncios que desequilibran sectores económicos tan importantes como es el sector del automóvil es gracias a ustedes gracias al pnv

políticos sin pensar en los intereses y en las necesidades de los ciudadanos vascos que ven peligrar su puesto de trabajo

no les competiera ustedes son los corresponsables de esta situación

qué piensan hacer para revertir esta situación de incertidumbre van a seguir apuntalando al gobierno de españa que nos arruina día a día

un momento en el que no sabía si me había retrotraído a mi época en el congreso de los diputados o estaba en el parlamento vasco de verdad

le entiendo es una intervención lo siento desde el despecho y si

entonces quizá tengan que hacer un poquito de autocrítica un poquito solamente de todas maneras si vamos a entrar como no pienso seguir con esta línea si vamos a entrar con el tema del diesel vamos a hacer un análisis

bastante correctos en primer lugar yo creo que tenemos que tener en cuenta

la situación en automoción concretamente parte yo diría de dos compromisos claros al que podemos añadir un tercero dos compromisos uno el de reducir las emisiones de ce o dos reducir las emisiones del ce o dos es un compromiso que por última vez se adquirió

en parís puesto que el ce o dos no en sí mismo contaminante pero hace que el efecto

emitimos demasiado ce o dos se vea incrementado por tanto

humana eso por una parte eso conduce a qué a que haya que adoptar también en automoción

y con todo tipo de actuaciones en segundo lugar hay otro compromiso

transitar a modelos más sostenibles energéticamente y por tanto ahí aparece el vehículo eléctrico y la necesaria sustitución de los vehículos de combustión interna por aquellos de tracción eléctrica hay países que los han asumido con mucho más

como pueden ser países casi que llamábamos del tercer mundo hace pero una china una india en estos momentos están haciendo una apuesta muy importante por el vehículo eléctrico bien con el objetivo también de reducir las emisiones de ce o dos

es que en determinados núcleos urbanos cada vez mayores por cierto porque las megaciudades en todo el mundo están adquiriendo una importancia relevante están decidiendo que

todo eso ha hecho que el sector de la automoción se haya modificado sustancialmente sustancialmente pero son sobre todo esos tres compromisos a ello tenemos que añadir algo que yo creo que un fabricante alemán que estaba

respecto a lo que estaba haciendo con sus motores diesel ha sido bastante hábil y ha cambiado el foco de las trampas que estaba haciendo tratando de

y hacer que todo el diesel se vea afectado y pasamos de las trampas de una empresa

hacen que aquellos motores que a partir de dos mil catorce se hayan puesto en marcha son mucho más eficientes por una parte y además contaminan mucho menos en qué sentido pues tal como usted decía cuando estábamos hablando de contaminación y también yo he leído el artículo del señor josu jon imaz y por lo tanto lo voy a utilizar unos datos que él decía

y su trayectoria personal en formación creo que pueden avalar los datos decía que cuando estamos hablando de contaminación en ciudades hablamos de

y en los vehículos diesel a partir de aquellos que llevan motores diesel diseñados y desarrollados a partir del dos mil catorce primero se han reducido las partículas más de en una proporción de uno a diez y en cuanto a emisiones

a una sexta parte son competitivos y son vamos a decir emiten prácticamente lo mismo que uno de gasolina luego demonizar un gasoil sobre una gasolina creo que es una situación un tanto

si hablamos de gases de efecto invernadero bueno podemos analizar también qué es lo que ocurre entre gasolina y gasoil podemos decir

luego estoy de acuerdo con usted en que efectivamente

tenemos que trabajar por renovar el parque de vehículos que en estos momentos se muevan no solamente por las ciudades sino

en trayectorias de más largo recorrido tenemos que renovar y tratar de que existan

previos al dos mil catorce sean sustituidos también hablábamos en la comisión hace escasamente quince días cuando presentaba el plan de movilidad eléctrica del gobierno y el señor otero aquí presente también me hacía una

que en muchas ocasiones hablamos de que electrificamos con el objetivo de reducir emisiones y de hacer el sistema mucho más sostenible pero no tenemos en cuenta de dónde viene

tiene que ir unido al mix eléctrico y tenemos que trabajar en ambos

luego ahí hay ámbitos en los que tenemos que trabajar y nos queda muchísimo recorrido tenemos que fomentar por tanto modificar los vehículos antiguos

el parque móvil y al mismo tiempo que el mix energético del que nos estamos nutriendo en este momento también se modifique hacia energías más sostenibles

es generar más incertidumbre de la que ya existe y sobre todo

de que todas estas actuaciones que se están llevando a cabo que vienen decía y me reitero en que alguien que hizo una trampa ha tratado de demonizar todo el diesel

todas estas declaraciones ubicadas en el estado español están en toda europa están en toda europa y existen múltiples intereses de otros países

en que en estos momentos la automoción de europa también se vea afectada y se vea reducida en su actividad tenemos que trabajar todos siendo conscientes de donde estamos yendo y esta misma semana la comisión europea tomó una decisión de que

sin duda usted lo ha leído se ha bajado a un cuarenta por ciento eso significa que el diesel es malo en sí mismo no nos hemos puesto unos objetivos mayores luego tenemos que proceder a una mayor electrificación

una mejora del sector del diesel y una mejora del parque móvil en toda europa en toda europa no solo ni en el estado español y no solo en euskadi tenemos que ser conscientes de dónde nos movemos y el sector de la automoción se está preparando en euskadi se está preparando y lleva tiempo preparándose y usted hacía referencia

a la única planta que tenemos de producción de vehículos completos que es mercedes en este caso

desde el punto de vista de modernización de la planta de digitalización y de producción de vehículos eléctricos de primer nivel bueno vamos a tratar de dar confianza entre todos no demonizando

una tecnología como es la nueva del diesel y haciendo esa transición energética

y de menos contaminación utilizando todo lo que está en nuestra mano así como décimos que energías renovables no podemos pasar del mix energético que tenemos ahora a tener todo renovable y hay que hacer una transición pues lo mismo tenemos que hacer una transición

lo más eficientes posibles y tratando de emitir lo menos posible pero insisto en el conjunto de la unión europea y en todo el mundo la cop veintiuno hablaba de compromisos mundiales

solo de euskadi luego vamos a ser conscientes de cuál es el problema en su conjunto y a tratar de identificar dónde están las dificultades y cuáles pueden ser las soluciones eskerrik asko

sí son ustedes corresponsables del gobierno que tenemos eso es un dato objetivo ni despecho ni nada realidad los votos suman en el congreso y los suyos son determinantes por lo tanto corresponsable que hay una situación de transición de los motores sí sí pero que aquí y eso no lo digo yo lo dice todo el sector del automóvil todo quien ha levantado la polvareda es cuando se nombra un impuesto a un determinado modelo de automóvil y eso ha frenado las ventas en seco porque en esa transición que estábamos llevando había una pequeña caída del tres o el cuatro por ciento y ahora estamos en el veinte

las palabras de este gobierno irresponsable del que ustedes son corresponsables

y eso es así y mientras no lo cambien seguirá siendo así señora consejera así que vamos a poner

y desde el grupo popular le trasladamos nuestra preocupación preocupación por esa factoría que afecta principalmente a vitoria y que sabe que son

empleos del sector de la automoción en vitoria

etcétera pero a vitoria es sangrante porque cuando hablamos de cuarenta y cinco mil trabajadores son cuarenta y cinco mil familias

porque mire ayer salió los datos del observatorio de proyecciones de empleo dos mil quince dos mil treinta y qué les dice ese observatorio qué les dice les enmienda la mayor les dice que en dos mil treinta se va a reducir

y qué sectores van a ser los que más empleo van a perder pues mira la industria manufacturera un catorce por ciento oiga y esta mañana que era ciencia ficción lo que nos estaban contando ciencia ficción se enmiendan ustedes que les dice su observatorio no es de fuera es de aquí el observatorio está claro señora consejera que el gobierno de españa

cambio y ustedes tienen en su mano el propiciar este cambio y que el gobierno debe

desde el primer ministro hasta el último porque todos han hablado y lo deben hacer público tratar de revertir la situación y señora consejera esto no es la arcadia feliz por mucho que el señor lehendakari engole la voz para decirnos que esto va como un tren pues no como le he dicho se les ha enmendado el observatorio de

de empleo de proyecciones de empleo dos mil quince dos mil treinta no nos engañen no vivimos gracias al pnv el país vasco no lo han inventado ustedes hay que decir la verdad su gestión

gastamos lo que no está escrito en innovación y el propio lehendakari reconoció aquí que no innovamos que estamos por debajo de los índices y usted sabe perfectamente los millónes de euros que dedicamos a esto y además

que nos arruina este gobierno también puede hacer cosas y tomar medidas digo su gobierno su departamento para tratar de frenar este deterioro pero usted no ha dicho una palabra en todo este tiempo no le preocupan los empleos de vitoria

no le preocupa me sorprende que no hayan hablado les veo entregados al gobierno de españa de verdad

una adoración vamos a protegerles para que nos duren mucho señora consejera tenemos que trabajar en la renovación del parque de viviendas dígale al señor lehendakari que no se cumple el presupuesto que hay una partida de cincuenta millónes de euros y que no se está aplicando no se pueda aplicar esa partida no pueden hacer nada ustedes para que se haga un plan de renovación en el gobierno de españa

y para frenar esta caída del sector ustedes lo pueden hacer son parte son corresponsables de esta situación

exijan al gobierno que cumpla las partidas o no les preocupan las partidas qué les preocupa señora consejera

de euskadi no se sienta en el congreso de los diputados ni en el senado siquiera todavía no quizá en algún momento nos sentemos pero todavía no y dado que usted está tan preocupada por cómo se ejecuta el presupuesto porque se hacen en el congreso de los diputados quizá en las próximas elecciones

está usted muy preocupada de lo de allí y de cómo se ejecuta el presupuesto de allí y de cómo se hace qué no se hace y qué dicen los ministros y qué no dicen los ministros

habla usted de impuestos especiales que resulta que el señor sánchez ha dicho que sus ministros han dicho pero es que impuestos especiales

muchas ciudades europeas se han puesto impuestos especiales a la entrada de vehículos contaminantes y creo que

ahora que usted me diga que porque una partida que hay que ejecutar estoy de acuerdo con usted para renovar

ayer en prensa venía que precisamente iba a haber un plan renove me imagino que se utilizarán estos cincuenta millónes de euros

el señor sánchez es un demonio por no utilizar estos cincuenta millónes de euros ni el señor rajoy hubiera solucionado el problema mundial de la automoción con estos cincuenta millónes de euros vamos a poner las cosas en su justa medida

que hay cosas que se pueden mejorar evidente todo es mejorable el concepto de mejora continua se acuñó hace muchísimo tiempo y todos

mejorables por supuesto y en la medida que podemos lo vamos haciendo por supuesto me dice también que los datos actuales el observatorio

cuando la señora artolazabal habla de datos de empleo habla a toro pasado

hoy hablará de los datos de septiembre en septiembre hablaba de los de agosto etcétera son datos

en función de macro tendencias y podrá ocurrir o no yo le estoy hablando de lo que ocurre hoy el ipi crece los contratos crecen el pib

el empleo crece y la afiliación a la seguridad social crece

tanto como crecen otros países que están creciendo al siete por ciento por supuesto por supuesto

iremos a un dos pues sí cierto también pero

está ocurriendo y no me diga que estoy mintiendo cuando los datos son fehacientes por tanto vamos a ser un poquito claros como usted me decía

y cada una de las ciudades de todas y cada una de las empresas y su actividad

por eso le decía no vamos a generar más incertidumbre de la que existe vamos a tratar de trabajar

en la mejora del sector de automoción que ya lo están haciendo por cierto sean una realidad mañana y por mucho que estemos invirtiendo en innovación y no consigamos todos los resultados que queremos hay que continuar invirtiendo en innovación

en innovación no tecnológica en mejoras de gestión en mejoras de participación de trabajadores en diversificación de negocio en muchas actuaciones y tenemos que ser persistentes y perseverantes porque el que hoy invirtamos muchos millónes en innovación no significa que los resultados vayan a ser a corto plazo y como no los tenemos a corto plazo

aumentar cada año un cinco por ciento la parte pública ahora bien a usted que tanto le gusta mirar los presupuestos de madrid

cuánto está creciendo o decreciendo porque también la inversión pública no solamente es del gobierno vasco es de otras instituciones

no es que tenga hoy futuro sino que dentro de diez años también esté perfectamente organizado para continuar en el tiempo eskerrik asko eskerrik asko tapia

el diecinueve de julio de dos mil dieciocho afirmaba señora consejera que el gobierno vasco ve voluntad absoluta y actitud abierta en el ministro de fomento para concretar y emprender

puertos aeropuertos ferrocarriles y que con respecto al tren de alta velocidad el señor ministro se remitirá a finales de otoño

el veinticuatro de septiembre en esta cámara señora consejera reconoció que con el cambio del gobierno central se ha producido un pequeño parón luego rectificó parón le pareció muy fuerte y vino a decir

importante y que esto no significa que esté estancado el proyecto y que no hay parón

señora consejera cuándo termina el retraso y cuándo empieza el parón ya hemos superado los tres meses que usted ponía como límite y

encontramos cómo valora esta situación señora consejera

eskerrik asko presidente anderea bueno quiero comenzar destacando que precisamente la obra del y vasca

un parón en este momento o un retraso o un retardo como usted lo quiera llamar la obra de la y vasca lleva teniendo un retraso desde el año noventa y cuatro es decir si nos remitimos al año noventa y cuatro cuando se produce la cumbre de y donde la y vasca es parte del corredor

y se dice que como corredor prioritario tendría que estar construido antes del año dos mil diez

es como mínimo de ocho años como mínimo de ocho años estamos en el dos mil dieciocho está sin construir y todavía nos queda un rato luego no es tres meses si vamos a ir al parón general van a ser alrededor de

más de trece y quizá se pueda aproximar a algo más luego vamos a ser conscientes desde que en bruselas se decidió

recientemente la comisaria bulc ha dicho que este corredor sige siendo prioritario que la y vasca sigue siendo prioritaria y que hay que ejecutarla desde el gobierno vasco siempre en esa voluntad de ejecutar esta infraestructura nos pusimos a disposición de utilizar el concierto económico para adelantar esas obras que el estado español estuviera quien estuviera en el gobierno tenía muy poca intención de hacer a día de hoy

es verdad en un cambio de gobierno siempre se produce eso pero desde luego siendo prioritaria como es en estos momentos se ha conseguido desbloquear el nudo de bergara

se está produciendo en estos momentos la licitación de la obra en la entrada de la ciudad de donosti

del señor sánchez porque desde que en bilbao por ejemplo presentamos la solución desde el ocho de marzo tenía que haber ido a estudio informativo el gobierno del señor rajoy salió en junio entre marzo y junio también se podría haber llevado a estudio informativo esa obra existe un retardo de esos meses por el cambio de gobierno

los estudios informativos tenían que estar a finales de dos mil dieciocho y no lo están pero no solo por el señor sánchez eskerrik asko

señora consejera cuente todo usted sabía que había una reunión el dos de junio y que en julio también se iba a hacer el estudio informativo por lo tanto

usted puso las transferencias por delante de las infraestructuras en la reunión con el ministro

hipotecados más de quinientos millónes de euros de inversiones para el país vasco en los presupuestos generales del estado

más de quinientos millónes de euros que ustedes han puesto en manos del partido socialista para que los gestione un tal sánchez que no cree en estas cuentas y que no ha llegado a moncloa para gobernar tendrá que explicar a los vascos

este despropósito se han equivocado a sabiendas eligieron pulpo como animal de compañía y así estamos pendientes de un hilo optaron por un gobierno

réditos para el nacionalismo ustedes no se les llena que se les llena la boca diciendo que con el gobierno de las personas y nombran un gobierno

oiga ustedes el gobierno de las personas pues para ser el gobierno de las personas los han ignorado nos han ignorado en este trámite

y han vendido el interés de una infraestructura tan importante para el país vasco como es el tren de alta velocidad aplazado

estaba avanzado con el gobierno de rajoy eso lo sabe usted

ven y la esperan como una oportunidad de crecimiento económico una oportunidad de desarrollo y lo necesitan cuanto antes y el retraso que usted nos ha anunciado de nada tiene

suyo suyo y no vamos a entrar porque fue un problema suyo de esta comunidad autónoma vale saben ustedes que un gobierno

pero no les gusta se sienten pequeños un gobierno débil en españa

y ahí llega el nacionalismo para recordarnos que vivimos gracias a ellos

a salvarnos esto no les importa sus

todo lo que se les ocurre es que se les ha acabado la paciencia les ha salido señoría

y son corresponsables de este fiasco y su responsabilidad es poner medios para solucionarlo cuanto antes señora consejera eskerrik asko

eskerrik asko presidente anderea señora lópez de ocariz le reitero el gobierno vasco no se sienta en el congreso quien se sienta en el congreso son los partidos como usted sabe y desde luego sus intervenciones la anterior y esta desde luego son puro despecho lo siento por usted por

nadie más ustedes son los máximos responsables en segundo lugar

doce de junio y ahí no iba a adoptarse todavía ningún estudio informativo yo le he hablado de que bilbao lo pusimos en marcha el ocho de marzo y desde el ocho de marzo hasta junio hubo tiempo de sacar el estudio informativo no se sacó pero no voy a entrar en ese detalle porque si usted quiere hablar de retrasos

la responsabilidad de este tipo de infraestructuras no es de gobiernos regionales es del gobierno del estado y desde el año noventa y cuatro

y si se puso en marcha fue gracias a que el gobierno vasco en ese caso puso la herramienta al concierto económico para acelerar la obra y usted lo sabe perfectamente casualmente

y recuerdo las palabras de una ministra que decía que íbamos a poner ese convenio en marcha por encima de su cadáver no es cadáver la señora pero es un cadáver político y esa infraestructura en este momento tiene un convenio por el cual el gobierno vasco está ejecutando

y si hablamos de retrasos vamos a hablar de todos y no del último momento y de verdad
hágase mirar ese despecho que tiene y tranquilícese un poco eskerrik asko eskerrik asko

para que no nos malinterpreten por ahí fuera o en europa en el resto de europa esta mañana le hemos oído al lehendakari hablar de crear

pero quizás debiéramos de empezar por mantener el que tenemos sobre todo si es bueno y sobre todo si hablamos de empleo industrial y si hablamos del sector

la naval es que para nosotros es muy importante pero no por la naval en sí mismo porque como alguien ya ha dicho antes la naval es un sector no es un astillero

por muy importantes que sean esos barcos y por muy inteligentes que sean esos barcos estamos hablando de un sector y estamos hablando no nos preocupan especialmente los trabajadores de la naval de eso ya nos ocupamos nosotros hace dos años

lo hicimos porque nos parecía importante que esa empresa no se descapitalizara humanamente porque si no se hubiera cerrado ese no es el problema

si para este gobierno de verdad es prioritario ese sector y es prioritario las empresas auxiliares en torno a ese sector y estamos hablando de cerca dos mil empleos que evidentemente no tienen recolocación

y la conclusión es que he sacado es que se puede intervenir en cualquier caso siempre que haya un inversor

concurso liquidación etcétera porque este problema es que está de antes es que hace dos años más de dos años todos sabíamos que había el problema

el último que parece que se entero fue el gobierno vasco bien usted nos dice que tiene solución siempre que haya un inversor

esta región de europa en este aspecto tiene las mismas competencias que cualquier estado nacional de europa tenemos competencias fiscales

a nadie más no necesitamos a nadie más

para salvar esos miles de puestos de trabajo que en realidad no se trataría de eso

a dejar caer un sector económico puntero como lo tenemos tecnológicamente en el país vasco

ya sé que no estamos para arreglar el problema del gasoil en el mundo

en general en el mundo pero sí el nuestro en nuestras empresas aquí

pero sí me gustaría que si el gobierno de verdad a parte de decirme que está buscando un inversor piensa hacer algo eskerrik asko

señor damborenea estoy de acuerdo con usted de que el sector naval en euskadi es importante y tenemos

en una situación en la que ninguno de ellos estaba en crisis si a crisis le llamamos concurso que es lo que se denomina vamos a decir en concepto de la unión europea pero sí estaban en crisis por una situación por la que el tax lease que

en aquel momento trabajamos con todos ellos para modernizar el sector para buscar nuevas actividades

buenos resultados a partir de ahí la naval que es

diferentes entra en concurso y en ese momento permítame reiterar mi intervención anterior en ese momento no es posible que intervengamos porque la única ayuda que se podía dar y repito lo que le he comentado al señor becerra ya la dio el estado en el año noventa y siete

luego en ese momento no hemos podido intervenir previamente sí y también lo el gobierno del señor lópez tomó la decisión de creo que ustedes lo apoyaban luego lo recordará igual que yo tomó la decisión de participar con cinco millónes de euros y los inversores privados no nos quisieron no quisieron nuestra participación

no pudo ser durante el proceso concursal no ha sido posible y ahora en liquidación si aparece un inversor privado ahora no siempre ahora es posible

estamos dispuestos siempre que aparezca ese inversor privado porque es cuando la normativa europea nos lo permite

en una parte de la naval pero no dependen absolutamente porque permítame la expresión agraria el monocultivo no suele ser interesante y nuestra empresa ya ha aprendido que tiene que diversificar en clientes luego se van a ver afectados es verdad la situación de concurso en la naval les va a afectar es cierto pero no por ello van a desaparecer y yo creo que tenemos que trabajar porque esas empresas

provean de actuaciones a otros astilleros que ya lo están haciendo y diversifiquen hacia otros sectores y es ahí donde tenemos que ayudarles a encontrar ese camino para que

no nos conduzca a una situación problemática en esta empresa o en cualquier otra que también hemos vivido eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea damborenea jauna zurea da hitza

señora consejera no voy a hacer historia

usted tiene capacidad de articular ese inversor usted tiene los fondos del gobierno vasco usted tiene las competencias fiscales usted las diputaciones forales mire las competencias fiscales

y este gobierno no sería la primera vez que articula un inversor en un sector empresarial que lo ha hecho siempre

que ha interesado y por lo tanto no me diga que estamos buscando
porque lo que tiene que hacer es articularlo y esa es la solución y lo sabe usted como yo eskerrik asko damborenea jauna denbora agortu zaizu

eskerrik asko presidente andrea señor damborenea hoy estamos en las palabras qué significa articular un inversor qué significa articular un inversor si articular un inversor es cuando la naval hubo que privatizarla buscar que ingeteam y murueta

lo que tenemos que hacer es buscarlo atraerlo conseguir

y coinvertir con ellos tanto el gobierno del estado como el gobierno vasco si los inversores privados quieren porque es que parece como si pudiéramos participar en cualquier empresa y podemos tener todos los fondos que queramos pero si el inversor privado

no nos quiere no podemos entrar es como que yo pretenda ir a cenar a su casa señor damborenea si usted no me abre la puerta no voy a poder ir luego vamos a ser capaces de

un inversor o varios inversores privados que tengan un plan que permita reflotar esa empresa y permita hacerla viable y vamos a coinvertir inversores esa es la voluntad de este gobierno me consta que es la voluntad del gobierno del estado por conversaciones que hemos mantenido con la ministra
y por tanto ese es el trabajo que nos toca hacer y creo que lo hemos reiterado tanto el lehendakari como yo en nuestras intervenciones de hoy eskerrik asko eskerrik asko tapia andrea

egun on guztioi este pasado martes hemos conocido una resolución de la agencia vasca de protección de datos sobre una denuncia presentada contra lanbide en relación al documento

esta resolución aclara que con ese documento ustedes han dejado a todas las personas que lo han venido firmando en estos años en lanbide en una situación de desconocimiento o indefensión

sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi señora guanche esta no es la primera vez que yo le respondo desde esta tribuna a cuestiones relacionadas con la protección de datos en lanbide

y trabajaremos para que las personas usuarias tengan garantizado el uso seguro responsable y acorde a la normativa exigente el caso que usted comenta sigue avalando esta afirmación porque la resolución que usted menciona de la agencia vasca de protección de datos desestima la denuncia ya que lanbide actuaba correctamente y conforme a la legislación en materia de protección de datos personales

clara que habilita a lanbide a realizar consultas o verificaciones de datos sin necesidad de recabar previamente el consentimiento de la persona solicitante por lo tanto no cabe ningún de actuación en los expedientes de las personas

ni vulneración de ningún derecho por haberlo hecho ya que viene recogido en la propia ley en su escrito de fecha cuatro de septiembre la agencia vasca de protección de datos

para el tratamiento de datos descrito en la denuncia si bien deberá modificar la cláusula informativa contenida en el anexo y esto es lo que hemos hecho ello confirma que no es necesario disponer del consentimiento de la persona interesada ya que existe habilitación legal incluida en la renta de garantía de ingresos en la ley de renta de garantía de ingresos para consultar datos
en otras administraciones o en otras entidades públicas y privadas eskerrik asko

yo sí que creo que la resolución hace un planteamiento en el que los derechos de las personas pueden verse vulneradas al que usted

egin beharko zenukete porque aunque vayan a corregir el documento resulta cansado ver cómo quieren avanzar sistemáticamente con un rodillo por delante y se ve en esto se ve en la propuesta de reforma de garantía de ingresos en la reforma de lanbide

paradas porque no logran llegar acuerdos con nadie ni con agentes sociales ni con sindicales ni con el funcionariado ni con los partidos

debería beneficiar paradas porque ambas pasan por encima de todos los que no son como ustedes como si el sistema o mejor dicho el país fuese de su propiedad hablamos de una queja de la agencia vasca de protección de datos pero no es lo único ha tenido usted el año pasado el dudoso honor de ser

solo se responde favorablemente al trece por ciento va a pasar lo mismo de ahora en adelante con la agencia de protección de datos porque señora artolazabal

de la burocracia que de facto obstaculiza el ejercicio de los derechos selectivos porque están aplicando medidas criterios papeleos burocracia y requisitos de una manera

están convirtiendo lanbide en un servicio de cierta impunidad para la administración y cuando corrigen

esta es la forma en la que su departamento coloca en el centro a las personas

a lanbide modificar sus prácticas por colocar a la ciudadanía en indefensión la agencia vasca de protección de datos y el ararteko por suspender

espiral de exclusión social en dos mil diecisiete ochocientos quejas y muchas recomendaciones no atendidas

en la pregunta que me ha realizado dice que hay más de ochocientos quejas que recibe el ararteko si lo comparamos con los más de doscientos mil actos administrativos que hace lanbide creo que es un porcentaje bajo pesar de todo seguimos trabajando para que eso se vaya disminuyendo y además sí que

este gobierno yo creo y además así lo manifiesto está actuando en el estricto cumplimento de la ley las personas no ven vulneradas sus derechos lo que la agencia ha hecho

y el hecho de que se haya archivado dicha denuncia es un claro ejemplo de que las cosas las estamos haciendo bien en lanbide además de cumplir con la normativa siempre buscamos la excelencia en la gestión que realizamos y señora guanche mire la actual ley de renta de garantía de ingresos recoge preceptos legales que legitiman

le aclaro que este segundo consentimiento que es de lo que estábamos hablando en la denuncia que se nos hace y que ha sido archivada por parte de la agencia

en su momento para realizar estos trabajos estadísticos

que se solicitara este segundo consentimiento y como consecuencia de esa denuncia lo que hace la agencia vasca de protección de datos y concluye es que lanbide

y que no es necesaria esa segunda autorización por lo tanto lo que nosotros hacemos es

nos la exigió lo que hemos hecho ha sido lo que nos dice la agencia decidir

no es obligatorio solicitar ese segundo consentimiento que nos exigió en su momento además dentro de lo que es la mejora que estamos desarrollando en lanbide vamos a ampliar la información que se les va a dar a las personas solicitantes

permítame que le pregunte están teniendo en cuenta usted y el gobierno del partido nacionalista

las consecuencias que tienen sus decisiones en los miembros de la comunidad educativa se pone usted en el lugar de las familias

como estas decisiones no le afectan ni a usted ni a los suyos le dan exactamente igual las consecuencias lo digo porque hay veces que escuchándoles tenemos esa sensación y en esta ocasión nos ocurre lo mismo ya sabemos

o mejor dicho la buena gestión en educación no es el punto fuerte de este gobierno pero no cree que sería importante ponerse en los zapatos de las familias egia esango dizut ohituta gaude gobernu honen jarrerarekin

que sus decisiones influyen en la calidad educativa de los niños y niñas vascas en la vida de las familias y en la conciliación y corresponsabilidad

es consciente de ello porque encima luego se preguntará

baja porque esto es lo que ha pasado con el transporte escolar de los niños y las niñas de dos años de la escuela pública

porque en este tema también existen diferencias entre redes

de que los colegios concertados no han puesto pegas a los niños de esa edad para viajar en los autobuses pero ustedes en la pública sí qué sorpresa qué es lo que realmente ha pasado

de que no estaba garantizado que los niños y las niñas de dos años viajasen en los autobuses con los dispositivos de sujeción adecuados quiere esto decir

de la seguridad en el transporte escolar pero es que

es que antes de preocuparse de buscar soluciones al problema este gobierno decidió dejarles sin transporte dejarles sin transporte sin transporte para los niños y niñas de dos años generando un problema grave para la conciliación y la corresponsabilidad en las familias

vamos a hacer un ejercicio de imaginación señora uriarte imagine que tiene usted uno de dos años y otro de siete qué haría si de la noche a la mañana le dicen que su hijo de dos años no puede montar en el autobús monta a su hijo mayo en el autobús y rápidamente va con el pequeño en coche

para poder llegar a tiempo al colegio y por la tarde recoge al pequeño y vuelve corriendo a casa para llegar antes de que el autobús llegue con el mayor

con el empleo con las tareas domésticas con el ocio con las extraescolares es cierto que la normativa vigente no incluye transportar a los niños y niñas de dos años pero antes de retirarles el servicio lo lógico no hubiese sido solucionar el problema buscar

sino que crean otro mayor ustedes parece que se han levantado una mañana y han dicho venga a partir de hoy se cumple la normativa hoy sí ayer no

sin prever los problemas que esto genera sin ofrecer soluciones de ningún tipo ustedes han salido de nuevo y a todo correr y sin pensarlo demasiado a decir que rectifican

y no es verdad señora uriarte ez da egia

lo que han hecho es pasar la pelota del problema a un tercero a los centros escolares se han lavado las manos diciendo

y citó literalmente bajo la responsabilidad de los centros estamos hablando de que el noventa y dos por ciento de los niños de dos años de euskadi

de cero a dos años acuden a centros de ambas redes y aunque no todos requieren de servicio de transporte escolar muchos de ellos sí y usted qué propone señora uriarte qué es lo que propone parece

siempre tarde se ha dado cuenta de que la decisión de retirar el transporte a los niños y niñas de dos años no fue evidentemente la decisión

que rectificar pero cuidado menuda manera de rectificar señora consejera cito otra vez literalmente sus palabras los alumnos de dos años de la escuela pública vasca podrán seguir utilizando el transporte escolar como lo venían haciendo hasta ahora siempre y cuando los centros educativos lo aprueben es decir rectifica sí pero de nada ha servido y nada

fuera hay colegios públicos que están pidiendo a las familias que firmen un documento en el que asuman la responsabilidad de lo que pueda ocurrir

cualquiera con un mínimo de conocimiento jurídico sabe que ese tipo de autorizaciones

en caso de que ocurriese algo pero es que además declara que no van a poner impedimentos a la prestación del transporte escolar

solo faltaba según dicen para el departamento de educación garantizar la seguridad de los escolares en su trayecto al centro educativo es una prioridad por todo ello

y urgentes va a adoptar el departamento de educación para responder a las necesidades de transporte escolar del alumnado de primer ciclo de educación infantil

qué va a hacer para asegurar que los niños y las niñas de dos años vayan seguros y seguras en el autobús concrétenos por favor señora consejera

a los centros no es clara es confusa y está generando mucho enfado como es normal entre las familias mila esker eskerrik asko

el año mil novecientos noventa y cuatro el cinco de octubre la organización internacional del trabajo y la unesco firmaron un acuerdo sobre las docentes a nivel mundial

el cinco de octubre es el día internacional del docente entonces nos van a permitir una pequeña introducción a mi intervención

en nombre de nuestro grupo nuestro respeto nuestro apoyo y nuestra consideración en su día internacional

este asunto normativamente deriva

que es el decreto sesenta y nueve barra dos mil quince de diecinueve de mayo firmado y que tiene por

no universitarios de la comunidad autónoma del país vasco financiado por el departamento competente en materia educativa es decir por la consejería de educación

este decreto regulaba efectivamente el transporte pero dejaba abierto había lagunas había cosas de las que no hablaba

entonces en esos huecos no cubiertos se coló que los niños de dos años

no su situación no estaba recogida en el decreto pero como excepcionalidad como situación especial lo usa

alguien autorizado de la consejería de educación comunica a los centros

por todo lo cual el alumnado de primer ciclo de educación infantil no está dentro del ámbito de aplicación de la normativa reguladora del transporte escolar es decir

de este decreto bueno estamos en marzo estamos en marzo

junio julio agosto y llega septiembre y en septiembre a los centros vizcaínos por lo menos se les comunica que si los niños menores de tres años van a utilizar el transporte escolar lo harían siempre su responsabilidad las palabras en algo que es normativo son muy importantes porque esto en realidad no quiere decir nada

y eso es la consejería de interior y se forma el caos

tienen periodos de adaptación con horarios de entrada y salida diferentes

cada cuatro o cinco días hay problemas en que hay varios hermanos uno de los cuales pueden usar el autobús y el otro no puede en fin y en la prensa aparece el dos de octubre quizás sea de época anterior pero aparece el dos de octubre

entre comillas da marcha atrás lo que se materializa en otro escrito a los centros permítanme lo tengo aquí

es que si acabamos todos en un conflicto lo escrito va a tener una importancia muy muy grande se dice que la consejería

obstaculizar desde el aplicativo no me pregunten que es el aplicativo

no va a obstaculizar desde el aplicativo que las direcciones de los centros

el transporte del alumnado de dos años dicha decisión deberá ser compartida entre los responsables de los centros educativos y las familias

como si se hubiera dicho que me imagino que sí que los periodistas lo habrán cubierto así en el correo leemos que en una nota de prensa se dice esta decisión de utilizar los autobuses lo harían los centros siempre bajo su responsabilidad mire en una nota de prensa no tiene eficacia

y en este escrito no viene de quien es la responsabilidad dice que no se va a obstaculizar

educativos y las familias no habla de responsabilidad señores si hay un accidente dios no lo quiera

una situación grave de quién es la responsabilidad

y de quien lo paga que es la consejería de interior

bueno y entonces los niños de dos años parece ser que vuelven a estar incorporados al transporte escolar claro

hasta el mes de octubre han pasado bastantes meses muchos de ellos estivales lo sabemos pero los ciclos educativos no coinciden con los ciclos de los trabajadores más habituales entonces han pasado muchos meses y en este decreto

una herramienta perfecta para solucionar estos problemas el decreto una comisión de seguimiento del transporte escolar y propondrá las medidas que se estimen adecuadas para mejorar el transporte escolar en todas sus modalidades e informará de las autorizaciones excepcionales a que se refiere el transporte escolar

y recursos materiales el director o directora de centros escolares el delegado o delegada territorial de educación la responsable de gestión económica y presupuestos el o la responsable de servicios complementarios y becas y el

de gestión económica es decir se crea un órgano precisamente para resolver estos problemas y verá por lo que les he leído que es un órgano al más alto nivel

desde marzo en que se expulsa a los menores de tres años del transporte escolar hasta septiembre

en función de lo que he expuesto que creo que es bastante objetivo quisiéramos formular nuestro grupo quisiera formular las siguientes preguntas a la consejera

hay un problema de seguridad en el transporte de niños de dos años o no lo hay

quiénes son los responsables quién ha contratado los seguros quién ha contratado el servicio de autobús quién lo paga quiénes son los responsables

esa que venía en el decreto que era una buena idea porque se puede hacer un decreto sobre un servicio pero las necesidades de servicio cambian las circunstancias

cuándo se ha reunido la comisión de seguimiento de transporte escolar para abordar este problema en qué

ha pedido informes técnicos como está capacitada a otros órganos o administraciones

y si ha sacado verdaderamente consecuencias y puede plantear

cuándo se van a poner en vigor muchas gracias eskerrik asko bengoechea andrea erantzuteko uriarte andrea zurea da hitza

todas estas actuaciones servicios directos ayudas individualizadas y servicio de acompañantes

que nuestro gobierno articula para atender adecuadamente las necesidades derivadas de la prestación del servicio complementario de transporte escolar con todas las garantías de calidad y seguridad y es importante ponerlo en valor como he señalado al principio de mi intervención acotando el asunto a las cuestiones planteadas

a través de los vehículos contratados para tal efecto en este sentido el marco normativo fundamental vigente para la prestación de este servicio

sobre el transporte escolar del alumnado de los centros docentes públicos no universitarios de la comunidad autónoma del país vasco financiado por el departamento competente en materia educativa un marco normativo

y que surgió fundamentalmente por la necesidad de integración en un único texto de todos los elementos necesarios para la prestación del servicio complementario de transporte

al alumnado usuario del servicio a sus familias y a los propios centros educativos aquí cabe destacar que hasta esta novedosa regulación no existía una norma que integrara toda la regulación de este servicio dekretuak jasotzen dituen berrikuntza nagusien artean

en este sentido el marco regulatorio del decreto se extiende únicamente a las enseñanzas de segundo ciclo de educación infantil educación primaria y educación secundaria obligatoria en los centros docentes públicos no universitarios y a los centros docentes de gestión

asimismo destacar que dicho decreto no estableció ningún cambio con respecto a la regulación anterior vigente hasta dos mil quince que recogía los mismos niveles de enseñanza

ziren eta ez dago bestelako aginduren berririk desde la implantación del decreto en dos mil quince

están establecidas tres formas de utilización de los servicios contratados en dicho decreto el primero de los casos como alumnado de pleno derecho aplicable al alumnado que cumple con los requisitos de zonificación y distancia establecidos en el decreto

se beneficia de una serie de derechos que tal calificación comporta como la cuota bonificada de comedor el segundo de los supuestos

situación debidamente autorizada por la comisión de seguimiento del transporte escolar que a tal efecto está establecida en el artículo doce del decreto y que garantiza la plaza

situación que no conlleva cuota bonificada de comedor

analiza e informa de las autorizaciones excepcionales propuestas por las delegaciones territoriales

el relativo al alumnado denominado autorizado que ocupa sitios libres sin derecho a plaza escolar y que es autorizado por el director o directora del centro

esta ha sido la operativa y no ha habido ningún cambio de criterio en el objeto y la aplicación del mismo berriz ere diot maiatzaren hemeretziko

aplikazioan el pasado doce de diciembre de dos mil diecisiete

y se informa a la dirección de gestión económica de la operativa de transporte de alumnado de dos años siguiendo unos criterios de priorización similares a los establecidos para el resto del alumnado

cabe insistir que este colectivo el de niños y niñas de dos años no está incluido en el ámbito del decreto y así se traslada en respuesta aclaratoria ofrecida el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete en este sentido señora bengoechea la comunicación trasladada a los centros en marzo de dos mil dieciocho

no viene más que a aclarar ser una nota aclaratoria de hecho de los preceptos del ámbito de aplicación del decreto

que es el vigente y establecido desde su publicación dicho lo cual

el transporte escolar constituye un factor que condiciona el ejercicio del derecho a una educación de calidad bajo los principios de cohesión y equidad

forma parte de las obligaciones que deben ser asumidas por la administración educativa en determinadas circunstancias y enseñanzas por otro lado somos conscientes que hay aspectos de mejora nuevas situaciones que requieren la adaptación de la regulación del servicio de transporte desde principios de dos mil dieciocho nos hemos puesto como reto la mejora del servicio

somos la comunidad autónoma que tiene mayor tasa de escolarización infantil a los dos años en torno al noventa y dos coma nueve por ciento dato de dos mil dieciséis

y debemos dotarnos de actuaciones complementarias que refuercen y sobre todo regulen y garanticen normativamente las necesidades de las familias de hecho

se recoge el planteamiento de abordar como un avance educativo y una oportunidad para progresar en la inclusión y la equidad la incorporación de dicho nivel de dos años al segundo ciclo
tres cinco años de la educación infantil y es en en esta línea en la que estamos trabajando eskerrik asko uriarte

le hemos preguntado por medidas urgentes urgentes

ha hablado de que a lo largo del curso se abordará la modificación del decreto dos mil quince que regula

cuándo y en qué sentido de verdad piensa que por rectificar y dejar montar en los autobuses a niños de dos años bajo la responsabilidad del centro

al menos por una vez hablar con las familias o nos vamos a encontrar otra vez con un decretazo en la comisión de educación como hizo con el decreto de matriculaciones

solicitan que se incluya en el decreto a los niños y las niñas del primer ciclo de infantil como transportados autorizados hasta ahora el alumnado del aula de dos años

como autorizados siempre que hubiese sitio y en el caso de no tener parada de transporte donde les correspondiese

a esto se refiere cuando usted habla de modificar el decreto

las familias también reclaman garantizar el número de plazas que haya plazas suficientes porque no sé si sabe

en zalla hay niños que se pueden quedar en tierra sin autobús en función de si hay plazas o no disponibles además de esto la plataforma vecinal gurasoak martxan de uribe costa pide

y las características técnicas de las homologaciones quieren que sus hijos e hijas viajen seguros

usted evidentemente y entiendo que sí querría lo mismo para sus hijos para terminar es el deber del departamento de educación y de este gobierno facilitar la conciliación a las familias y ofrecer calidad educativa

de entorpecerles su día a día crear confusiones en los centros y poner más barreras una vez más nos encontramos ante un departamento de educación que demuestra con sus actuaciones que sigue sin rumbo y que actúa en base a quejas de las familias y esto
no es normal mila esker eskerrik asko

señora uriarte vamos a ver usted dice que esa comunicación a los centros no cambiaba nada del decreto

cuando no existía más que el decreto antes de esa circular los niños de primer ciclo de infantil iban en el autobús bajo la modalidad

sí y cuando ustedes mandan la circular

estos niños no están cubiertos por este decreto

comunican eso o sea que los expulsan pero mire eso ni tan siquiera es lo más importante

y veo que la hemos preparado con los mismo documentos

pero claro no me ha contestado a las preguntas que le he hecho usted se acuerda

dicho que dice contra el vicio de pedir la virtud de no dar

mi obligación mi virtud es la de interpelar y entonces yo en este caso diría contra la virtud de interpelar el vicio

no me ha contestado usted a las preguntas y para nosotros estas preguntas son importantísimas

hay un problema de seguridad en el transporte de niños de dos años o no lo hay esa es la pregunta principal es incluso la pregunta que puede avalar que en marzo se expulsara a los niños de dos años de la cobertura del decreto

porque eso es lo fundamental ahora bien lo que no puedo compartir señora consejera es que no se dé

ninguna opción porque pasan seis meses que usted tiene

a las dos nos parecía importantísima y la herramienta para solucionar este problema y en seis meses qué ha hecho esa comisión de seguimiento qué ha hecho porque yo le voy a decir una cosa que se me ocurre

dice que hay varias formas de proporcionar el transporte una la que veníamos usando hasta ahora que es la que ha generado problemas que es mediante rutas de vehículos contratadas por el departamento competente o sea por ustedes otra mediante convenios con otras administraciones que puede ser el transporte municipal

y una tercera mediante transporte directamente sufragado por los alumnos y alumnas compensado total o parcialmente a través de convocatorias subvencionables y asignaciones individualizadas de transporte escolares vamos a ver esos niños

incluso en vehículos particulares bien dotados los padres se podrían poner de acuerdo podríamos tener una iniciativa ahí o en la fórmula de taxis o algo así porque tenemos un contrato con los autobuses y hasta que ese

las condiciones en las que se adjudicó ese contrato no se pueden poner sillitas

a los autobuses normales entonces qué ha hecho esa comisión de seguimiento en estos ocho meses qué solución ha propuesto

hay un problema de seguridad en el transporte de niños de dos años o no lo hay el segundo muy importante

dios no lo quiera quiénes son los responsables quiénes pero quién paga el transporte

que los niños viajen el tercero cuándo se reunió la comisión de seguimiento de transporte escolar para abordar este problema en qué fecha y qué informes técnicos de otras entidades tienen ustedes para llegar a una solución

es mi virtud por favor convierta su vicio en virtud y contesteme muchas gracias eskerrik asko

señora bengoechea creo que simplemente escuchándoles no me han escuchado atentamente porque yo creo que

en respuesta a sus preocupaciones y sus preguntas y tal y como he comentado en mi intervención anterior somos conscientes de la necesidad de avanzar incorporando nuevas medidas durante la aplicación operativa del decreto nueve barra dos mil quince durante el periodo de vigencia

y nuevas demandas necesidades a través de la comisión de seguimiento que se reúne regularmente sobre todo cuando llegan todas las solicitudes por parte de las delegaciones

en lo relativo a distancias zonas tratamiento específico de zonas rurales y también llegan solicitudes de la extensión del servicio al alumnado de dos años en un proceso de mejora continua se trata de esa manera de reducir las situaciones excepcionales

en este sentido les comunico que estamos trabajando como he dicho antes en un nuevo borrador de decreto desde primeros de año

complementará y clarificará los supuestos de aplicación en aras de una mayor eficiencia y simplificación administrativa en nuestra relación con las familias y las direcciones de los centros

en relación a las dudas suscitadas en la interpretación de la literalidad del decreto el pasado veintiocho de septiembre la delegación territorial

trasladó a los centros indicaciones específicas como ustedes han citado es decir

en base a su criterio y autonomía de centro puedan autorizar el transporte del alumnado de dos años dicha decisión será compartida entre los responsables de los centros y las familias

es decir que no hay modificación alguna en el proceder que hasta ahora han venido haciendo y desarrollando desde las direcciones de los centros no ha habido ningún cambio como he señalado en el ínterin desde el departamento estamos trabajando en la modificación del decreto

en la incorporación de las niñas y niños de dos años en el ámbito de aplicación del decreto porque no están recogidos

y de ser así en las medidas de seguridad que debieran cumplirse siendo prioritario para este departamento la seguridad de nuestras niñas y de nuestros niños

hablamos con las familias y con las direcciones de los centros que hemos hablado antes y hemos hablado recientemente

el departamento de educación continuamente está analizando posibles medidas que refuercen la seguridad en el transporte escolar

el transporte de los niños de dos años no está regulado no está recogido en la normativa

leer la prensa ayer había un buen artículo en el periódico

a sus preguntas es decir quién es responsable quién deja de ser responsable nosotros hacemos la contratación de los itinerarios hau da

porque como administración nos corresponde regular y garantizar primando la seguridad la prestación del servicio complementario de transporte escolar del alumnado de centros públicos

novedosa regulación lo que hay que oír vaya novedosa

hamargarrena artikulua da acompañantes de autobús en las rutas

como puede ser la inclusión del alumnado de dos años en dicho servicio complementario y en ello estamos trabajando desde principios de año como he comentado antes somos la comunidad autónoma que mayor tasa de escolarización infantil tiene a los dos año

y debemos dotarnos de actuaciones complementarias que refuercen y sobre todo regulen y garanticen normativamente las necesidades de las familias horrela planteatzen dugu akordiorako

sailburuak compañeros y compañeras parlamentarias

es una pregunta al consejero de salud directa y sencilla por qué ha cesado o ha autorizado el cese al doctor rafael gracia ballarín

al de un tiempo de salir en los foros un documento firmado por más de quinientos sesenta médicos

proponiendo cambios para la mejora de la atención primaria en osakidetza

cesó o autorizó el cese del mencionado médico de su puesto como responsable por qué lo ha hecho eskerrik asko

el puesto por el que usted me pregunta es el de responsable de la unidad docente de medicina familiar y comunitaria de araba un puesto técnico como usted bien sabe

procedía al nombramiento del doctor rafael gracia porque la dirección

consideró que era el profesional adecuado en aquel momento concreto yo también era el consejero en aquel momento transcurridos cinco años desde su nombramiento

renovar el liderazgo en el desempeño del puesto y adecuar el perfil a los nuevos retos del mismo

de la misma forma y con idéntico criterio es decir nada especial

como responsables de programas mandos intermedios y directivos son de carácter temporal tienen un inicio y es sencillamente lo que ha ocurrido escuchamos con frecuencia a su grupo político que ustedes no han venido para perpetuarse

estoy completamente de acuerdo con ustedes en ese criterio no estamos aquí para siempre

bakartxo andrea señor consejero aquí nada se mueve sin que usted lo autorice

empiezan cuando se les nombra y acaban cuando se les cesan es así la vida en todos los aspectos de la vida y de la administración pública el pasado mayo orain dela bost

cesó al doctor rafael gracia médico de familia responsable durante cinco años de la unidad docente de medicina familiar y comunitaria

en euskadi secretario de la junta directiva de osatzen

de euskadi de la que fue su presidente durante más de cinco años

varias asociaciones profesionales colectivos sociales y cientos de médicos de familia han pedido que rectifique

ha sido un error ha sido un importante error en su carrera profesional y política usted mismo es miembro de osatzen

ha sido un comportamiento soberbio no en el sentido de magnífico sino en el sentido de celotípico una actitud difícil de entender

a más de diecinueve jefes de servicio de hospitales sobre los que hay evidencias de que han participado directa y explícitamente en el fraude

algunos jefes de servicio que me han llamado honrados la mayoría

cesa a líderes de atención primaria y promete su reforma es una falta de respeto señor darpón hoy va a llover a la noche

lloverá y yo veré como usted rectifica antes de que acabe esta legislatura algunos errores de calado que está cometiendo algunas torpezas

lloverá y yo veré cómo algunas cosas cambiarán en osakidetza a su pesar es cierto como confirmó el lehendakari que la federación de asociaciones para defensa de la sanidad pública de la que soy ha considerado que el país vasco es el mejor servicio sanitario de las diecisiete comunidades autónomas

que no hay por dónde meterle la cuchara cuando salga prescrita repásela en el caso concreto porque usted ha preguntado

no influirá mi actitud personal hacia el doctor que usted ha mencionado la dirección de osakidetza consideró importante adecuar el perfil profesional

con el mismo o equivalente prestigio y ninguna queja al respecto y por lo tanto

con los líderes de la atención primaria sea usted respetuoso

del proyecto formativo que tiene encomendado y si no le aconsejo también que hable con los residentes de medicina familiar y comunitaria de araba y con el resto de sus compañeros mire

y además comparto el interés por la mejor formación de los futuros especialistas en medicina familiar y comunitaria por eso estamos mejorando el programa por eso

y por eso ha venido otra persona a continuar y estoy seguro de que usted debiera compartir los criterios no solo
de boca sino también de hechos eskerrik asko eskerrik asko darpón jauna

señora presidenta buenos días buenas tardes ya casi a todos

consejero nuestra televisión pública tiene un presupuesto de ciento diez millónes de euros del que el noventa por ciento noventa y ocho millónes de euros proceden de los presupuestos

departamento es decir que casi cien millónes de euros que cuesta etb salen del bolsillo de todos los vascos frente a ello con la actual dirección la conexión de entre etb

mediante las audiencias ha alcanzado sus mínimos históricos con datos que he recogido

tuvo una audiencia de dos coma dos por ciento un veintiuno por ciento menos que en agosto e te be dos siete coma nueve por ciento por debajo del ocho por primera vez en este año dos mil dieciocho y etb hiru cero coma tres por ciento un cuarenta por ciento menos que en agosto estos son los resultados que puede ofrecer esta dirección

una dirección que se mantiene no precisamente por los resultados sino que se mantiene con respiración asistida con respiración política asistida por pura conveniencia política y mientras esa conveniencia persista los vascos seguiremos una televisión pública mal gestionada absolutamente alejada de la realidad de los vascos en la que todo se decide en función del criterio político

y ante esto qué se hace pues nada mirar para otro lado

porque el traslado de la reunión del consejo de administración de e i te be a pamplona es eso un capricho político porque yo le pregunto señor consejero qué necesidad había de llevar el consejo de

a todos los vascos a su departamento cuánto nos cuestan las desconexiones que presuntamente se van a hacer en navarra cuánto nos va a costar a los vascos van a poner algo los navarros

presidente andrea legebiltzarkide jaun andreok egun on bueno yo pensaba que la pregunta que se me formulaba era

para trasladar la reunión del consejo de administración de e i te be a pamplona

aunque creo que no debo hacerlo señora llanos como usted bien sabe

corresponde a quien ostenta la presidencia del mismo según el artículo trece de la ley de creación de e i te be

no corresponde al gobierno vasco conocer las razones de esa decisión ni requerir información sobre la misma eskerrik asko eskerrik asko

a navarra también le he preguntado por lo que iban a costar las desconexiones que

y usted no sé si me va a decir cuál es la justificación de que e i te be emita

es por el tema del idioma por el tema del euskera eso sí ahora e te be dos también está emitiendo en navarra y por qué

traslada el consejo de administración a navarra y por qué esa

pues porque se explica atendiendo al credo nacionalista

y por eso se utiliza como instrumento ese traslado del consejo de administración a navarra se quiere trasladar la imagen de que e i te be es la televisión pública no de euskadi sino de esa euskal herria que no existe de la que navarra formaría parte por ello intentan convertir etb no en la televisión

de euskal herria y que intentan que sea la televisión pública de navarra eso sí sin que a los navarros por lo menos por lo que sabemos en otras cuestiones lo que hay es una utilización política de e i te be de instrumentalizarla al servicio de un interés político identitario como le digo ante la falta de euskal herria

euskal herria de las ondas esa muestra de una pose política

señores del pnv se las pagan ustedes con su dinero no con el dinero de todos los vascos

es una televisión pública en la que todos los vascos todos nos veamos representados
donde haya una gestión profesional donde los criterios no se decidan en la sede política de un partido eskerrik asko llanos anderea zupiria jauna zurea da hitza

no es la primera vez que el consejo de administración de e i te be se reúne en iruña y además consta

creo que es normal que el consejo de e i te be mantenga la costumbre de reunirse en las diferentes sedes que tiene tanto en bilbao como en miramon como gasteiz o como en iruña

en cuanto a la recepción de las señales de radio y televisión en navarra el propio parlamento de la comunidad foral en representación de la soberanía

ha demandado en más de una ocasión la normalización de la captación de e i te be y ese interés se ha concretado

tanto en tiempos del lehendakari lópez con el apoyo de su partido como

que una comunidad que comparte con nosotros dos lenguas oficiales

y cuyos ciudadanos además muestran interés por los contenidos informativos

televisión y radio de e i te be pidan mejorar su captación

una parte importante de la sociedad navarra ha hecho múltiples esfuerzos incluso personales

para que estas se recibieran con normalidad en la comunidad foral vecina y la razón principal de que esta demanda haya estado presente desde el comienzo y el motivo regularización ha sido objeto de acuerdo entre los gobiernos vasco y navarro es uno y principal y no es otro que la voluntad de la sociedad navarra de recibir con naturalidad las emisiones de radio y televisión
emite en euskera y en castellano eskerrik asko eskerrik asko

balio behar duela erantzun behar diola no vivimos en términos globales en una época de vacas flacas en la época de vacas flacas de gran crisis económica que hemos padecido en los últimos años con unos descensos bruscos del pib

pero por lo menos se podía justificar pero ahora estamos en una época de crecimiento macroeconómico estamos creciendo al tres por ciento y ese crecimiento no se está repartiendo de manera justa

de este país va a responder la mesa de diálogo social a ese reparto justo de la riqueza que se está creando va a responder a las necesidades de precariedad de

a la pérdida de poder adquisitivo de los salarios de la conflictividad de la negativa de la patronal a firmar convenios que reflejen verdaderos avances para los derechos de los trabajadores y trabajadoras solo algunas cuantas pinceladas sobre esa realidad a la que tenemos que hacer frente

y el cuarenta por ciento tiene un convenio prorrogado esto son los datos de finales de dos mil diecisiete aunque ha mejorado algo

y de esos trabajadores que tienen convenio ha aumentado un veinte por ciento los que están bajo el paraguas de un convenio estatal en términos generales supone menor cobertura y peores condiciones que los convenios de ámbito vasco que han descendido el número de trabajadores cubiertos por esos convenios en un treinta y cinco por ciento en cuanto a los incrementos salariales en dos mil diecisiete la media de subida de ese año fue de un uno coma cuarenta y siete

uno coma cincuenta y siete estoy dando datos del informe que conocerá perfectamente

dos mil diecisiete esto significa que con una inflación del dos por ciento tanto los que traían un convenio anterior

firmando o disfrutando entre comillas subidas salariales

de poder adquisitivo y además aunque se incrementaron

de la conflictividad laboral se multiplicó tanto el número de huelgas como de jornadas como de participantes en huelgas a lo largo de dos mil diecisiete con respecto al año dos mil dieciséis es decir lo poco que se consiguió

en el número de huelgas y eso es importante cuando hablemos de la confrontación o no confrontación hay que entender que lo poco que se consiguió habría que decir que se arrancó

incremento de la movilización y la conflictividad laboral y un último aspecto un cuarto aspecto de este retrato de las relaciones laborales del país la precariedad siguió creciendo en sus dos principales facetas la temporalidad y el trabajo parcial

sube ya a un veintiocho coma tres por ciento y es el máximo de la serie del eustat

con un trabajo temporal fíjese cada persona que tuvo un contrato cada persona que pasó por las oficinas de los servicios de empleo y firmó allí un contrato en realidad su media de contratos fue de tres coma ocho al año

firma tres contratos al año lo que da pie a hablar de una profunda inestabilidad el trabajo parcial es otro problema serio el veintisiete por ciento de los asalariados y asalariadas está trabajando con un trabajo parcial y además aquí se ve de una forma muy notoria la brecha entre hombres y mujeres el veinte

y el cuarenta por ciento de las mujeres tiene un trabajo parcial por lo tanto vemos cómo a pesar de que el año

que el anterior todavía tenemos graves problemas de falta de renovación de convenios de aumento de la conflictividad de incrementos salariales que no suponen mejoras sino pérdidas de poder adquisitivo y de una precariedad creciente y esto por qué pasa pues pasa lo hemos dicho en otras ocasiones porque hay una patronal bloquear la negociación colectiva para imponer estas condiciones y aumentar su tasa de beneficio y pasa porque esa patronal tiene una legislación laboral hecha ad hoc para que pueda hacerlo y también pasa y ahí está su responsabilidad porque tenemos unos gobiernos ahora en el estado español ha cambiado y habrá que ver como se posiciona pero el gobierno vasco yo creo que ha sido también participe de esa realidad tenemos unos gobiernos que frente a esta realidad cruda

de estos déficits que acabo de señalar sea alineado de forma

les ha secundado permanentemente en todas sus políticas restrictivas de derechos

de plantar cara a esa patronal no solo no es capaz de plantar cara a la patronal aquí podemos firmar un acuerdo en este parlamento en el que se pida una subida generalizada de los salarios pero luego no es capaz de trasladarle a la patronal con la suficiente asertividad con la suficiente seriedad

harto de esta actitud de la patronal para poder hacer moverse a esa patronal al contrario ustedes siguen

delegando en la patronal la elaboración de las políticas públicas de carácter económico

en manos de confesbak poco más o menos y entonces así es muy difícil que se tomen en serio a este gobierno e incluso a este parlamento

por un modelo de diálogo social que realmente cuente con los representantes de la mayoría de los trabajadores que se tiendan puentes serios y honestos hacia los que no están y que además
vaya a responder a toda esta problemática y no se quede en una simple escenificación eskerrik asko casanova jauna san josé anderea zurea da hitza

eguerdi on guztioi señor casanova me interpela sobre si este gobierno tiene la intención de modificar el modelo de mesa de diálogo social que impide la participación de los sindicatos mayoritarios y bueno en esto

distinta interpretación voy a tratar de responderle siguiendo un esquema y una argumentación mediante la cual espero

que defiendo que defendemos dentro del gobierno y las diferentes formas en que pueden articularse y la realidad que estamos

nos alegramos de tener índices que nos sitúan a la cabeza de las regiones de europa en muchas cuestiones que tienen que ver con el estado de bienestar social

como son la educación y más concretamente la formación profesional como tiene que ver con la sanidad con la innovación con la esperanza de vida y con la renta media por citar algunos sin embargo

que en nuestra comunidad la salud del diálogo social no está a la altura de esos indicadores sociales el problema no es fácil es complejo por lo que no se admiten soluciones sencillas o simples

respuesta desde la responsabilidad que asumimos cada una de las partes voy a partir de la definición

como es la que ofrece la organización internacional del trabajo que dice textualmente cito el diálogo social comprende todo tipo de negociación consulta o simplemente intercambio de información entre los representantes del gobierno los empleadores

sobre temas de interés común relativos a la política económica y social por lo tanto

en la participación tripartita es un modelo de referencia y que en el caso del gobierno vasco asumimos como válido y no consideramos conveniente modificar puede complementarse con otras formas de diálogo social como son las relaciones bipartitas entre empleadores y los representantes de las y los trabajadores pero en ningún caso puede eludirse la implicación de los gobiernos aunque como usted sabe aquí tenemos otros órganos

el diálogo social necesita responsables públicos con voluntad política de impulsarlo y de agentes sociales que actúen como sujetos activos en el mismo

con la función que les asigna el artículo siete de nuestra constitución que les califica como organismos de máxima relevancia que contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios

en cualquier sociedad moderna y avanzada como es la nuestra es el mejor mecanismo para mejorar las condiciones de vida y de trabajo y es un instrumento que permite avanzar hacia la justicia social y desempeña un papel crucial en el reto de conseguir la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres

mutuo en una relación de igualdad no existirá diálogo social si alguno de los actores imprescindibles se considera con más relevancia o derechos que otro

las partes integrantes pero no la voluntad integradora y esto es evidente a la luz de las declaraciones de alguno de sus representantes sociales promover el diálogo social por delante de la confrontación es una característica de las sociedades que evolucionan

no el motor de la historia no es el enfrentamiento señor casanova es el consenso esto no quiere decir que deba restringirse el derecho a las reivindicaciones y a las movilizaciones que sirvan para defenderlas

que permite que las sociedades crezcan en términos económicos sociales y de derechos pero esta no puede imponerse será fruto del diálogo

el respeto a los derechos fundamentales de la libertad sindical y la negociación colectiva

imprescindibles para que sea posible el diálogo social habitualmente el diálogo social se identifica con la forma más cercana como es la negociación colectiva

se plasman en convenios colectivos en este caso el papel de los gobiernos es el de impulsor no tiene una participación directa en la misma y aquí le tengo que decir señor casanova que en cualquier momento que he tenido ocasión de reunirme con la patronal esto es lo que les traslado en el modelo tripartito sí se reclama la participación directa de los gobiernos

tal y como se recoge en las directrices de la oit y en diferentes iniciativas que promueven las instituciones europeas el diálogo social debe servir para que las políticas públicas se adapten y den respuesta a las demandas reales y concretas de la ciudadanía muchas de las que usted ha planteado

en la justificación de su interpelación decía que el gobierno ha realizado dos movimientos

cito textualmente la elaboración del decreto que supondría la institucionalización de la mesa señoría el proyecto de decreto al que usted alude no es un movimiento en el sentido de cambio de lugar o de posición es consecuencia de una trayectoria larga es la conclusión y materialización de un acuerdo alcanzado en la mesa de diálogo social algo que se planteó en la reunión de la misma el veintidós de julio de dos mil dieciséis

con un compromiso logrado en el seno de la mesa de diálogo social y estamos haciendo un ejercicio de responsabilidad institucional y respondiendo a una demanda de la sociedad a requerimiento de un grupo de esta cámara hemos remitido hoy mismo el proyecto tal y como lo enviamos a los agentes sociales

como podrán comprobar no es un decreto complejo no es extenso y su análisis no requiere

si se aceptan los principios del diálogo social le avanzo que hemos recibido aportaciones

estamos examinando la forma de incorporar algunas de ellas al texto y que

contaremos con un proyecto definitivo este decreto de institucionalización en la comunidad autónoma es un instrumento necesario para consolidar la concertación y los acuerdos alcanzados y por alcanzar en la mesa de diálogo social el objetivo que pretendemos es garantizar

y jurídico que posibilite la intervención de sindicatos y organizaciones empresariales más representativos en los procesos de elaboración y diseño de las políticas

tal y como se recoge en el proyecto la mesa de diálogo social se pronunciará sobre los planes estratégicos los planes departamentales los proyectos de ley normas de carácter reglamentario que incidan en las relaciones laborales en la negociación colectiva o en cualquier otra de carácter

en ese marco se podrán proponer modificaciones sugerencias o aportaciones de interés para los agentes sociales que enriquezcan las iniciativas del gobierno antes de ser puestas en práctica creo que con esta iniciativa estamos posibilitando la elaboración de propuestas compartidas y ganando en calidad democrática

desdeñado su trabajo calificándolo de haber obtenido nulos resultados no estoy de acuerdo con usted y le voy a poner algunos ejemplos de esa importancia en la reunión de mesa de dieciocho de julio de dos mil diecisiete se reconoció por parte de los agentes sociales

al respecto de la formación profesional había supuesto un gran avance y la posibilidad de llegar a un amplio consenso que ha permitido la aprobación de la ley vasca de formación profesional y que indudablemente reportará beneficios al conjunto de nuestra sociedad

del papel que jugó esa reunión de veintidós de julio es que se logró

y territoriales finalmente este

el acuerdo interprofesional firmado también por organizaciones sindicales que no acuden a la mesa de diálogo social otorgaba prioridad a los convenios colectivos

de ámbito estatal que pudieran concurrir en mi opinión es un caso claro de beneficios que aporta el diálogo social no hay modelos de diálogo social contrapuestos unos a otros existe una forma de entenderlo

como es el de priorizar los intereses generales de los particulares desde el departamento de trabajo y desde el gobierno vasco apostamos por la vía de diálogo y la concertación
en el seno de instituciones bipartitas para avanzar y mejorar la calidad de vida de nuestra ciudadanía eskerrik asko

pues casi empiezo por el final señora consejera porque usted me dice que en enero de dos mil diecisiete se firma el acuerdo de estructura en el que por cierto y tal y como ha reconocido

sindicatos que están fuera de la mesa del diálogo social y por tanto no tienen una relación directa con esa

pero aun habiendo firmado en enero de dos mil diecisiete ese acuerdo de negociación colectiva

los que le he dicho anteriormente que un veinte por ciento más de trabajadores y trabajadoras estaban afectados por un convenio de ámbito estatal y un treinta y cinco por ciento menos estaban afectados por convenios de ámbito vasco por tanto ahí lo que me muestra son precisamente

y de ciertas actitudes que luego no se vienen correspondidas por hechos en la práctica y quien no quiere quien no quiere desarrollar este ámbito de negociación es la patronal

es la patronal y a quien hay que hacerle la presión es a la patronal invitándole seductoramente al consenso si usted quiere pues la verdad es que hasta el momento los frutos de esa política han sido bastantes escasos

es el motor de la historia y no la lucha de clases ni la confrontación no voy a entrar

regalos pocos por parte de la patronal regalos pocos y conquistas muchas y las conquistas

con lucha y si ustedes se ponen al lado de los trabajadores y trabajadoras a conquistar derechos mediante la lucha será más fácil si ustedes se ponen al lado de la patronal a decir que aquí somos todos amigos y que si no hay diálogo será porque no se enteran y dividen responsabilidades y es que este sindicato dice tal y este cual lo mezclan todo en un totum revolutum y al final lo que están haciendo es lavar la cara a la patronal porque usted quizás no crea en determinados principios del marxismo pero yo lo que le voy a decir igual le sorprende pero yo creo que hay gente en la patronal en confebask que sí cree

a ver si se le ha escapado alguna forma de explotación y le pueden aplicar porque realmente si vemos los resultados usted hablaba de liderazgos sobre europa

también en paro también en temporalidad y como le decía con un crecimiento del tres por ciento

inadmisible es inadmisible y su gobierno que esboza quince retos de legislatura pues como le hemos dicho en muchas ocasiones lo que se olvida es de los difíciles y de los importantes

el sueldo que entra en cada casa cada mes y quien está negándose a un aumento justo proporcional posible y coherente con la evolución de la economía quién es ela es la patronal

y ustedes evidentemente tienen que tener una relación institucional

pero también tienen que tener una relación institucional con el mundo sindical yo a usted no le exijo que se lleve bien con todos los sindicatos porque me parece complicado

pero sí exijo a este gobierno que tenga relaciones con los sindicatos y que tienda puentes y que sepa encajar críticas y que no rompa relaciones por que le critican a su gobierno

ugt a un gobierno del psoe se le levanta de la mesa si usted no lo llama pitote

de contradicciones públicas entre el señor lehendakari y usted han conseguido qué

a la casilla de salida y no es que yo diga que haya pocos resultados los partidarios de esta mesa de diálogo social incluso en la prensa le dicen la resolución del diálogo social es una buena noticia aunque venga precedida de los pobres resultados

a su modelo de diálogo social incluso ellos partes del reconocimiento de que se ha conseguido muy poco aquí hay

obstáculos para hacer un diálogo social real un diálogo social que resuelva los problemas

el marco el marco jurídico político que impide que la mayoría democrática de esta cámara pueda legislar sobre aspectos que inciden en el día a día de las personas y también en las relaciones laborales

un proceso de diálogo social que atienda los problemas y que sea realmente incisivo y no contemplativo y complaciente

confebask y en tercer lugar la composición de la propia mesa que margina a un sesenta por ciento de trabajadores y trabajadoras que no encuentran un punto de enganche

mínimamente normalizadas con el gobierno gu behar dugu hemen marko propio bat

aquí no se trata de a quién quieres más si a papá o a mamá

si no ha habido problemas que sí que los ha habido ha habido problemas pero desde luego

desde el gobierno todos los esfuerzos posibles para solventarlos y reconducir la vía del diálogo social porque esa es la vía que bueno pues que articule un marco estable en el que puedan integrarse todas aquellas representativas del mundo socio laboral que así lo deseen y desde luego nosotros entendemos y usted insiste en fijar la representatividad de cada organización sindical en el decreto y no quiere entender el diálogo social basado de tres partes y eso es lo que debe primar con esta iniciativa desde luego el gobierno

de más participación democrática a su gestión y a la planificación de sus políticas de esta manera los agentes sociales van a ser coparticipes de políticas socio laborales que se determinen y esto es lo que vamos a ofrecer a través de ese decreto no conozco tampoco ningún decreto ninguna ley

repito ninguna ninguna ley ni ningún decreto dialogar entre todos y acordar y que el acuerdo sea unánime es la base clave para el diálogo social y que este diálogo sea fructífero como lo fue la implantación del contrato de relevo como le he dicho en mi primera intervención hemos

para su aprobación de un desarrollo procedimental de consultas informes y es lo que estamos haciendo en este momento todos ustedes conocen las alegaciones de algunas organizaciones sindicales porque las hicieron públicas incluso antes de remitirlas al propio gobierno de verdad usted cree que esas alegaciones presentadas por alguna organización sindical son

salvo alguna muy específica opiniones sobre la política general del gobierno calificarla de neoliberal sobre la necesidad de cambiar la fiscalidad u otras cuestiones pueden considerarse

consideraciones generales o críticas legítimas pero no caben desde luego

una formulación articulada y precisa la consideración del carácter de más representativo o no de las organizaciones sindicales no es fruto de la improvisación

y nuestro deseo es que todas las organizaciones sindicales más representativas de euskadi participen en la mesa de diálogo social y estas son lab comisiones y ugt créame

concluir que vulneramos el reconocimiento de ninguna mayoría justo lo contrario ponemos a disposición de todas las organizaciones un instrumento que sea capaz de acordar mejoras políticas para los trabajadores y trabajadoras y para el conjunto de la sociedad que es precisamente lo que usted estaba reclamando

y hablo de responsabilidad como lo es hacerlo en otros órganos institucionales como los bipartitos como el consejo de relaciones laborales o el consejo económico

invito a todas las organizaciones más representativas a participar en todos ellos de la misma forma que algunos

lo hacen en otros de ámbitos geográficos superiores y voy terminando estamos elaborando este decreto y

que en el diálogo social está la clave del éxito y de las mejoras para todos los trabajadores y trabajadoras

le preguntamos hoy si este gobierno y

tienen intención de analizar y de conocer en profundidad

de las jornadas de trabajo que viven las y los trabajadores de este país porque pensamos que hay una contradicción entre muchas de las cosas que su departamento afirma y la política que este gobierno realiza respecto a las condiciones de trabajo de las y los trabajadores y pienso que

esa realidad hoy no hubiera sido tan categórica en el anterior punto al negar la existencia de la lucha de clases porque la lucha de clases que no es ir a tirar piedras al patrón la lucha de clases es la pelea económica política e ideológica entre dos clases

para las empresas las y los trabajadores somos un coste somos un gasto y procuran minimizar ese coste ese gasto y no solo en salarios

pero de manera muy importante precisamente en que trabajemos el máximo tiempo posible

y por eso existe una realidad en euskadi en la que no se concuerda la realidad de la legalidad de las jornadas de trabajo con la realidad de las jornadas reales de trabajo que hace la gente en este país y es algo que además usted misma reconoce

no vemos acciones concretas para abordar esta realidad por eso le preguntamos hoy si tienen intención de bajar al barro y conocer esa realidad dura
que viven miles de trabajadoras y trabajadores respecto a las jornadas de trabajo eskerrik asko eskerrik asko hernandez jauna

señor hernández se constata una vez más su preocupación por el control de las horas extras que se trabajan en nuestra comunidad y una vez más le respondo que comparto su preocupación y espero que coincidamos en las actuaciones necesarias para que ese control sea más efectivo

de analizar la realidad de esas jornadas de trabajo reales en nuestra comunidad

valiéndonos de las herramientas que tenemos pero como le explicaré más adelante no solo analizamos sino que actuamos a través de la inspección de trabajo transferida

laboral y las horas extras que se realizan en nuestros centros de trabajo para el estudio general contamos

y nuestras conclusiones no pueden ser más rotundas las y los trabajadores vascos realizan un excesivo número de horas extras sobrepasando lo establecido en la norma y lo que puede ser más grave

se hacen sin que los trabajadores y trabajadoras lo deseen e incluso en muchos casos sin ser remuneradas creo que estaremos de acuerdo que esto afecta negativamente al empleo y a los derechos de las personas trabajadoras
mesedez isiltasuna la medida más eficaz para incidir en esta anomalía es el control
incluyendo lógicamente el de las horas extras la legislación vigente el estatuto de los trabajadores tiene algunas lagunas al respecto

y además tenemos la sentencia del marzo

a bankia de llevar el control horario de sus trabajadores y trabajadoras ante esta situación

para que no haya lugar a dudas al respecto del control de la jornada por parte de las empresas también está

tiene que resolverse en el congreso de los diputados y en marzo del año pasado se aprobó en dicho congreso una proposición

hoy está pendiente de debate la proposición de ley presentada por el grupo parlamentario socialista

esta proposición de ley fue tomada en consideración en octubre del año pasado y precisamente el martes acabó el plazo de enmiendas espero que cuando se sustancie el debate de la mayoría la respalde y que esta modificación propuesta

de cada persona trabajadora otro de los instrumentos con los que contamos para poder evitar
la explotación laboral que supone el descontrol de la jornada laboral mesedez isiltasuna son

de la inspección de trabajo eskerrik asko eskerrik asko

sí señora san josé al igual que la otra ocasión usted me da dos respuestas

hablar de la legislación y de la normativa laboral donde ya sabe usted que podemos tener puntos en común y donde desde luego cuando el partido del que usted forma parte se decida también a impulsar esos cambios pues seguramente seguramente no que cuando se atrevan a derogar la última reforma laboral pues encontrarán el apoyo de izquierda unida y de unidos podemos

porque este fraude masivo que existe también se daba antes de las reformas laborales el fraude del abuso de las horas extraordinarias y del abuso de las jornadas de trabajo y por otro lado porque usted o su departamento tienen una serie de responsabilidades

es que actúan a través de la inspección de trabajo y nosotros lo que hemos visto a través de las solicitudes de información que les hacemos es que ustedes funcionan de manera ordinaria a través de las actuaciones ordinarias de la inspección de trabajo y nosotros lo que vemos es que hay una

por parte de su departamento de abordar esta cuestión y cuando nos hemos dirigido también a otro departamento que tendría algo que decir sobre esta cuestión que es el de empleo se nos dice que si nos conocemos fraudes en materia laboral que lo denunciemos yo espero

como el resto de miembros de su gobierno pero nosotros lo que constatamos es que no hay una actuación de este gobierno para abordar esta cuestión que se aumente en diez o en veinte el número de actuaciones de inspección de trabajo no va a acabar con un problema que usted misma en esta tribuna reconoció que está muy extendido en nuestras empresas y que tiene

que actúen que tengan un plan con objetivos que no se trata simplemente de una serie de actuaciones de inspección de trabajo que muchas veces no llegan a la realidad de las

y que la inspección de trabajo transferida mantiene abiertas dos campañas relativas al tiempo de trabajo y a las horas extraordinarias y además de preocuparse de estas cuestiones

por esta u otras causas en el primer semestre se han revisado diez mil novecientos noventa y nueve de los contratos a tiempo parcial

la inspección incumplimientos de la normativa hoy mismo va a recibir la respuesta escrita que formuló sobre el mismo asunto que nos ocupa

la inspección de trabajo ha realizado más de cuatrocientos treinta actuaciones en materia de tiempo de trabajo y horas extraordinarias habiéndose detectado cincuenta y nueve infracciones
que han sido sancionadas con sesenta y seis mil seiscientos ochenta y dos euros besterik ez eskerrik asko eskerrik asko